el próximo lunes plantearé al presidente del gobierno español sí

entre los dos gobiernos y lo haré comenzando por aquellos temas que cuentan con un mayor consenso en este parlamento y entre las instituciones vascas la primera

decirlo es contribuir a la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo de calidad

para ello es imprescindible consolidar en los presupuestos generales los programas de formación para la cualificación del empleo desarrollados

o el plan de garantía juvenil son objetivos prioritarios

defina un horizonte cierto para las transferencias pendientes el informe aprobado el veintisiete de septiembre del año pasado dos mil diecisiete remitido a la ponencia de autogobierno

está elaborado con una orientación constructiva tratando de facilitar la viabilidad de los traspasos por otra parte es importante avanzar en un nuevo modelo de estado

abre la puerta a un diagnóstico compartido y a un nuevo modelo asentado en el reconocimiento mutuo la relación basada en el pacto y la concertación y por último contamos también con un amplio consenso en la necesidad de poner fin a la excepcionalidad de la política penitenciaria y abrir una etapa de construcción de la convivencia normalizada desde la colaboración entre las instituciones vascas y del estado encuentro una nueva disposición
y espero avances en este sentido eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehendakari los acuerdos que estamos logrando en la ponencia de autogobierno son avances

un estatus que se tiene que vasar en una relación de igual a igual con el estado español

permite gestionar la pluralidad ideológica de este pueblo poniendo al mismo nivel todos los proyectos políticos la voluntad de la ciudadanía ha de ser el único límite la voluntad política es la que posibilita los avances o los bloquea y la legalidad puedo y debe ser la guía que posibilite

esperamos sinceramente que traslade a pedro sánchez el compromiso de la sociedad vasca por el autogobierno basado en el derecho de decidir un derecho con una honda raíz democrática
que recibe un tratamiento también democrático eskerrik asko urizar jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor urizar me ha parecido entender en su intervención primera y en la segunda y sobre todo en esta segunda que no ha prestado atención a lo que ha sido la pregunta que me ha formulado el señor egibar y la respuesta que le he ofrecido en cuanto a las intenciones con las que voy

del gobierno español en todo caso y por no repetirme pues le he respondido también haciendo caso a lo que han sido sus valoraciones positivas

o la posición en relación al futuro del autogobierno y han mencionado ustedes soluciones políticas le suena verdad señor urizar

es el primer paso para debatir sobre un nuevo modelo de estado al que he hecho referencia en mi primera intervención un modelo que se base precisamente en la asunción de las distintas realidades nacionales

y un nuevo modelo de relación concertada con el estado autogobernuaren

egun on mis primeras palabras son para lamentar el

y también una nueva decisión judicial injusta al final deja claro que es necesario una revisión profunda de la justicia

ante los derechos demandas y necesidades de las mujeres lehendakari jauna le pregunto hoy sobre el papel de su gobierno ante la situación del astillero la naval

qué medidas va a impulsar su gobierno para garantizar el futuro de la naval

yo prefiero también empezar por contestarle que el gobierno ha mantenido un papel muy activo en el seguimiento de la situación de la naval y no solo en esta legislatura señor martínez comenzando desde la pasada legislatura la situación es

muy complicada especialmente después de que la empresa se declarase en concurso de acreedores en octubre como consecuencia de las pérdidas acumuladas desde el ejercicio dos mil dieciséis le puedo asegurar que hemos estado en permanente contacto con todos los agentes

accionistas trabajadores armador acreedores y entidades financieras el objetivo es contribuir a dar salida a una situación que reitero

el quince de junio tras una compleja negociación entre el armador van oord

entidades financieras acreedoras se llegó a un principio de acuerdo para terminar la draga buque vox alexia en la naval de confirmarse el acuerdo y esto es lo que está en estos momentos en discusión se habrá conseguido una solución adecuada para todas las partes el acuerdo definitivo garantizaría una carga de trabajo de veinte meses para el personal directo de la naval y la industria auxiliar en el caso de que se confirme

el astillero retomaría la actividad y ganaría el tiempo necesario para buscar una solución definitiva no es sencillo por los problemas de rentabilidad

ya que me pregunta seguirá contribuyendo de forma activa a que esta solución sea posible algo que exige la implicación de todas las partes para buscar nuevos inversores comprometidos con plan industrial viable a medio plazo eskerrik asko

su gobierno no es prioritaria la implicación a fondo en la actividad de la naval con su industria auxiliar y con empleo directo e indirecto que genera a nosotros nos preocupa enormemente esa posición

es cierto que puede que haya una continuidad en la construcción del único barco que queda en la cantera de la naval pero sin embargo las incertidumbres son demasiadas como para dejar en manos del mercado estas industrias estratégicas yo lamento decir que hemos llegado a esta situación en parte debido a la falta de implicación de su gobierno en este asunto y le voy a poner una serie de ejemplos en el mes de octubre la salida del astillero cablero

en febrero de este año la salida de la draga vox amalia rumbo a cantabria para ser terminado allí en marzo la pérdida también

tal como se ha establecido en el preacuerdo entre el armador y los bancos el astillero ya no gestionará los contratos

en la margen izquierda la actividad en el astillero se ha reducido al mínimo

cuando la naval entra en concurso ya solo queda uno la draga vox alexia cuando para uno un óptimo rendimiento de las instalaciones se requiere tener tres barcos en proceso simultáneamente y se han perdido contratos

lo deseable sería que el gobierno que su gobierno se implicara de verdad en los próximos retos que se avecinan el astillero tiene que salir aún del concurso de acreedores se tienen que dirimir la responsabilidad de los accionistas y queda mucho trabajo por hacer

que ya debería estar hecho o al menos planificado y no lo está usted sabe que no es necesario que la empresa salga del concurso de acreedores para que haya un apoyo financiero

recogen el sentir de la plantilla y de los sindicatos pero sobre todo recogen una experiencia de gestión que ya existe una experiencia que evidencia como solamente el apoyo público permite avalar

solamente con apoyo público existe capacidad de impulsar la contratación que interesa a la construcción naval vasca solamente con financiación pública y social

anticípese trabaje de verdad para planificar la continuidad pública de la naval no tengan ustedes actitud de esperar a que les toquen la puerta para actuar su gobierno lleva meses jugando a hundir la flota con la naval aún estamos a tiempo

no se vaya a pique y la responsabilidad es de su gobierno de momento parece

del mayor astillero de euskadi está a tiempo de mostrar compromiso

que tienen soluciones no dejen a estos trabajadores a la deriva

o se está dando una discusión en el consejo de administración del armador con las posiciones encontradas que se están dando también en el consejo de administración y que el gobierno vasco hemos remitido un escrito a la parte positiva

de la construcción de la draga o del buque y también lo ha hecho el comité el gobierno está comprometido y activo en la búsqueda y captación de nuevos inversores que garanticen la viabilidad

suya la declaración del parlamento de once de mayo que solicita a las instituciones públicas y privadas y a todas las partes la máxima responsabilidad y colaboración

de veinte meses para una salida viable y estable eso sí nos corresponde actuar de forma rigurosa y responsable que es lo que usted no quiere entender como sabe

por la comisión europea y la dirección general de la competencia ya nos ha advertido de que actuará ante cualquier ayuda de estado señor martínez se lo he dicho

hace unos meses se planteó por ejemplo el problema de la empresa cel hoy gracias a la colaboración de todos los agentes

el gobierno va a seguir en contacto y con un papel activo en todos los casos de empresas
en dificultades se lo puedo asegurar eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

guztioi la regeneración urbana es uno de los objetivos que está perfectamente plasmado en la ley de vivienda del año

especialmente centrado en la recuperación en la regeneración de barrios vulnerables un proyecto que va mucho más allá de lo que puede ser la mejora de la accesibilidad la mejora ambiental la sostenibilidad

o la recuperación de nuevos espacios públicos va mucho más allá porque no afecta únicamente a la

vida de nuestros ciudadanas y ciudadanos sino que más allá de eso también redunda

en el impulso al sector dedicado a la rehabilitación de la vivienda su departamento tiene experiencia en estas usted como consejero también lo tiene ya que en su etapa anterior mismo departamento impulsó proyectos de regeneración y de rehabilitación de vivienda en varios barrios de euskadi

uno especialmente exitoso como por ejemplo el del barrio de mogel de eibar que puso de alguna manera la base o sentó la base para continuar línea y que no deja de ser también un claro ejemplo de lo que debe ser la interinstitucional la colaboración también con los vecinos y vecinas de dichos barrios y el fortalecimiento por qué no decirlo también del asociacionismo vecinal el pasado día quince su departamento presentó junto con el ayuntamiento de bilbao un acuerdo alcanzado para abordar un proyecto de regeneración en el barrio bilbaíno de otxarkoaga un ambicioso proyecto manera también pone de manifiesto el impulso y la apuesta de su departamento por estos proyectos por tanto me gustaría que como consejero nos

como qué planes piensa desarrollar en este ejercicio su departamento

la regeneración y renovación de los barrios más desfavorecidos es uno de los ejes de actuación de nuestro departamento y ello no solo porque la ley de vivienda marque una apuesta clara por intervenir la ciudad ya construida y renovar sus viejos edificios para hacerlos admisibles y eficientes energéticamente

porque entendemos que no es compatible una euskadi

con la asistencia de áreas urbanas que se quedan al margen de la modernidad

y es por ello que estamos actualizando el inventario de barrios vulnerables atendiendo una serie de indicadores como son la antigüedad y el estado de los edificios la accesibilidad la renta el empleo la salud la edad de las personas la eficiencia energética etcétera hemos empezado ya a actuar en dos líneas una la elaboración de un plan de intervención integral que contemple todas las actuaciones necesarias

y además la puesta en marcha en algunas de esas áreas urbanas

la regeneración integral que estamos proponiendo por supuesto como usted bien decía todas estas operaciones únicamente tendrán éxito

en estrecha colaboración con los ayuntamientos afectados y de la mano de los vecinos y asociaciones que viven en esos barrios

y prestándoles la ayuda adecuada en el dos mil dieciséis

en vitoria gasteiz el año pasado dimos los primeros pasos para iniciar las intervenciones en el barrio de txonta de eibar con doscientos veintiuno viviendas y

y la semana pasada como usted ha comentado presentamos junto con el ayuntamiento de bilbao y las asociaciones vecinales

donde se va a actuar sobre doscientos cuarenta viviendas

contaremos con un plan de financiación y ayudas para que nadie se quede fuera por falta de recursos

encauzar los proyectos y gestionar las ayudas como ventanilla única en los próximos meses

para ciento veintiocho viviendas el barrio de iñigo de loyola en irún para ciento setenta y ocho viviendas y el barrio de la esperanza de lasarte oria para ciento sesenta

las operaciones en curso afectarán a mil cuatrocientos treinta y tres viviendas

de la rehabilitación de edificios en materia de accesibilidad y eficiencia energética implica también la renovación y recuperación de espacios públicos

y la reurbanización de zonas degradadas y además planteamos acometer medidas de impulso a la cohesión social actividades de emprendizaje

y generación de actividad económica ligada a las labores de rehabilitación porque consideramos que aun siendo muy importante no se regenera un barrio solo renovando

el medio físico es básico pero también es importante el impulso de la actividad

señor lehendakari buenos días señorías verá el pasado diez de junio se organizó

en favor del derecho de autodeterminación que unió las tres capitales vascas en esa cadena y en ese festival que se hizo aquel día participó el presidente del partido al que usted pertenece

importantes cargos también del pnv representantes institucionales de primer nivel de las instituciones vascas todos pertenecientes a su partido fue recibido por la propia presidenta de este parlamento donde reside la representación de los vascos y que parece que tendría que ser un parlamento que nos represente a todos

de lo que puede ser un futuro que se avecine que se aproxima a euskadi

se pidió una contribución a los bares que quisieran este movimiento a cambio dijeron que los iban a decorar es decir que iban a etiquetar a los buenos y a los malos a los amigos y a los enemigos a los que apoyan y a los que no apoyan y por tanto que detrás de ese movimiento

hay una intención de dividir de iniciar un camino de ruptura y naturalmente de etiquetar a los vascos los que son nacionalistas los que no son nacionalistas los que desde su punto de vista creen en la libertad de euskadi y los que no creen en ella

y también lo estamos viendo en otros lugares y creo que es su responsabilidad como lehendakari explicarnos aquí hoy cuál es su posición

de que no iniciemos un camino de ruptura de euskadi eskerrik asko alonso jauna

no formulada por escrito y que me la formula verbalmente ahora en tribuna ya le he contestado y creo que mis

el objetivo de la cohesión social también en un ámbito de convivencia normalizada en todo caso y en relación con la pregunta que sí me formula por escrito y por la que usted ha empezado mire no me corresponde a mí valorar la participación o no de representantes institucionales en la cadena humana de gure esku dago

que en todos los casos se ha producido con absoluta transparencia naturalidad y responsabilidad cívica respeto a quien ha decidido acudir

no hacerlo y le pido a usted el mismo respeto y con relación a la carta de la que usted ha hablado también es de justicia reconocer

inmediatamente de este tipo de comportamientos y solicitó disculpas públicas por lo tanto no generemos polémicas interesadas donde no debe haberlas eskerrik asko

el problema señor lehendakari es que cuando usted habla de cohesión social yo le he creído

ingenuidad de confiar en ustedes

pero yo la pregunta que me hago ahora es qué razones nos quedan a nosotros para apoyarles qué razones tengo yo para seguir confiando

para diseñar un estatus soberanista exclusivamente con eh bildu ustedes dos solos con exclusión de sus propios socios de gobierno y del resto de la cámara han buscado también y han construido una mayoría no solamente

para derribar el gobierno con el que acababan de pactar una semana después han construido también esa mayoría no han apostado por la estabilidad han buscado un gobierno débil al que usted va a ir el lunes

a darle la agenda a marcarle los deberes del proyecto nacionalista en el que están embarcados

qué razones tengo entonces para apoyarle qué razones tengo para confiar en usted todo lo que usted dijo sobre la estabilidad se ha desmentido ustedes han elegido nos han orillado seguramente les parecemos poco importantes pero esta es la pregunta que yo me hago hoy y la respuesta que yo me doy es que no me quedan razones para confiar en el pnv

que el proyecto que están llevando adelante es un proyecto malo para euskadi que es un proyecto solo para el diecisiete por ciento de los vascos que apoyan la independencia y que es

hoy para mí un motivo de tristeza en esta legislatura que termine este periodo de sesiones y que después de los años de colaboración y yo se lo digo con pena
le tenga que decir que al partido popular no le queda ningún motivo para seguir confiando en usted eskerrik asko

señor alonso qué tiene esto que ver con gure esku dago bien

sí pues si alguna vez lo había hecho le diré

del gobierno de coalición partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi y me guío por cumplir lo que he comprometido y lo que he comprometido es unos presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco aprobados entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

y eso es lo que me obliga como lehendakari el cumplimiento del compromiso con el programa de gobierno de coalición y el cumplimiento con el compromiso del proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco y le doy mi palabra que lo voy a cumplir a partir de ahí

creo que vienen derivadas de lo que ha sucedido en el congreso de los diputados pero el mejor reflejo de la causa de lo que ha sucedido en el congreso de los diputados

del partido popular señor alonso no busque culpables en otras formaciones políticas sobre que les afecta a ustedes y únicamente a ustedes al partido popular en cualquier caso ha hablado también de la ponencia de autogobierno

y le diré y también vinculándolo con lo que ha sido la reivindicación de gure esku dago conviene recordar que este parlamento sí cuenta con una ponencia

y plantear una propuesta para su profundización y actualización y esta ponencia ha recibido también los planteamientos de gure esku dago como ha recibido de muchos otros

un acuerdo amplio y esa responsabilidad le corresponde también al partido popular señor alonso desde luego creo que en mayor medida que a gure esku dago que era la razón por la que usted me preguntaba hemos escuchado las voces de la sociedad y ahora señor alonso este parlamento representativo este parlamento

debe definir una propuesta institucional acordarla pactarla y lograr que sea ratificada por la sociedad vasca es la tarea que nos corresponde a quienes representamos a la sociedad vasca y por la que tenemos que dar respuesta creo que no me corresponde insisto

a las imputaciones que usted ha hecho mi compromiso es programa de gobierno cumplimiento de la palabra dada cumplimiento del proyecto de presupuestos eskerrik asko eskerrik asko

trabajan conjuntamente para incrementar la presencia económica de la unión europea en esa región del mundo dentro de ese marco tecnalia

que va a provocar la privatización de ese centro con

a usted le parece que esta actuación de tecnalia cumple con los principios establecidos en la estrategia vasca de internacionalización gracias eskerrik asko

gauza asko aipatu dituzu nazioartetzea proiektu europar bat ez dauka zerikusirik horrekin en el tema del que usted me habla se comenzó a comentar

a inicios del año dos mil dieciocho y como miembros del patronato de una fundación privada

de la que disponemos coincidiendo con la visita institucional que se realiza desde el ministerio de producción de argentina

ese ministerio se pone en contacto con tecnalia es recibido por tecnalia a solicitud suya dentro de un benchmarking que se estaba realizando por parte del ministerio no en ese proyecto europeo proceder a modificar la situación y analizar qué tenía que ser el inti transitando de los servicios tecnológicos que se estaban ofreciendo hacia un centro integral

en el mes de julio se produce una reunión a partir de ahí también existe otra reunión

se decide que sea tecnalia por parte del ministerio argentino porque

que entienden que es interesante a partir de ahí tecnalia realiza una oferta que es

proceder a realizar ese trabajo y entrega las conclusiones de su proyecto en enero de dos mil dieciocho en ningún momento se recoge nada asociada con una reestructuración sino que se habla de un proyecto en el cual se tiene que analizar qué va a ser el inti desde el punto de vista de servicios a la industria repito

un centro similar a lo que es en estos momentos tecnalia

el propio presidente argentino dentro de su política de reestructuración

nada que ver con el trabajo realizado por parte de tecnalia pero no lo digo yo desde el propio ministerio

leer textualmente lo que dice para que quede claro

deseo dejar claro que en ningún momento ha sido nuestra voluntad utilizar el nombre

sobra decir que la reestructuración del personal del inti nunca

y aprovecho la oportunidad para manifestar nuestra satisfacción con el trabajo realizado por tecnalia y con el resultado obtenido en esta colaboración es por ello que deseamos además dar continuidad a la relación en el marco de nuestra alianza queda bastante claro

son palabras del ministerio respecto al trabajo realizado por tecnalia eskerrik asko eskerrik asko

señora tapia le agradezco sus palabras y desde el respeto que le tengo también me voy a seguir dirigiendo al lehendakari porque esto

por eso yo le he mezclado con la estrategia vasca de internacionalización usted dice que tecnalia es una fundación privada tecnalia forma parte de la corporación tecnalia de la cual

en el patronato de la fundación están miembros del gobierno vasco

por lo tanto no se puede decir que tecnalia no tenga nada que ver con este gobierno todo lo contrario usted ha dicho que lo que hizo tecnalia fue simplemente

tecnalia a través de su masterplan ha hecho toda una estrategia de reestructuración que incluyó reuniones viajes visitas presenciales e incluso talleres de trabajo

y la adjudicación se hizo a dedo la prensa

nos ha referido le llamó utilizar un lenguaje corporativo entre liviano y esperanzador pero en el fondo lo que proponía tecnalia

en este caso los dirigentes del instituto nacional de tecnología industrial

pone los medios y luego el gobierno los ejecuta y eso tiene un coste y eso tiene un coste que al día siguiente de hacerse la presentación de este plan conllevó el despido ya de doscientos setenta personas

con su hija porque no solamente aquí hemos tenido víctimas que son personas hemos tenido también niños y niñas treinta niños y niñas que han sido despedidos también de la guardería

y aquí lo que tenemos es que tecnalia con su actuación no solamente

por todo un país a día de hoy tecnalia está

de acuerdo con unos principios de la estrategia vasca de internacionalización que dicen exactamente la internacionalización de euskadi debe promover un desarrollo que permita dar satisfacción a las necesidades de la sociedad vasca y que sea compatible con las necesidades humanas en otros países y territorios qué hacemos privatizando

en ámbitos como los alimentos los recursos naturales y la energía que son básicos para la soberanía de un país yo le digo a día de hoy que los principios que está defendiendo

los del oportunismo y los del afán de lucro y le digo también

que en su día acogió a muchos vascos y vascas en dificultades lo único que le puedo decir es que en mi opinión

tecnalia no nos representa eskerrik asko becerra jauna erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea señor becerra si usted prefiere hacer caso a lo que dice la prensa italiana frente a lo que

se envía como información dentro de una carta que le he leído y que además dice otras cosas que también le voy a decir

en ningún caso asociado a la reestructuración como le he dicho pero si usted prefiere hacer demagogia diciendo que tecnalia ha hecho lo que no ha hecho allá usted allá usted con su problema

y tecnalia ha hecho una labor crucial en este momento para definir lo que tiene que ser el instituto de investigación a partir de ahí el gobierno decidirá cómo lo tiene que hacer

señores consejeros señorías señora consejera le interpelo en nombre del grupo popular referente al sector agroalimentario vasco y su contribución eficiente a la agenda dos mil treinta y los ejecutivos de desarrollo sostenible es propósito de naciones unidas trabajar para que todas las personas en el mundo tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar

las principales necesidades de los más pobres quince años después

aprobaron la agenda dos mil treinta que plantea los objetivos de desarrollo sostenible un nuevo horizonte con diecisiete

que precisan la colaboración de la sociedad civil de los sectores públicos y privados y cuyo éxito significará un mundo más amable más igualitario

un alto impacto en el mundo dado que da respuesta a una de las necesidades básicas de la población que es el acceso a la alimentación por esto agroalimentario tiene efectos directos sobre el bienestar y la salud de los consumidores las condiciones de vida y el trabajo de millónes de personas

económica y medioambiental y por lo tanto en cada uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible también

importante son al menos treinta los retos y metas que afectan al sector agroalimentario en relación con los objetivos de desarrollo sostenible así han sido identificados a nivel del estado español por un grupo de agentes de la cadena alimentaria que han trabajado profundamente en esto y

retos y metas importantes que afectan al sector agroalimentario un sistema agroalimentario

seguros saludables y de calidad a la población debe gestionar adecuadamente la producción la extracción

naturales respetar el medio ambiente en sus actividades promover y proporcionar dietas variadas y equilibradas y saludables generar beneficios económicos y sociales y trabajar bajo criterios de sostenibilidad y a la par

de toneladas de alimentos al año de los treinta retos transversales identificados en la totalidad de la cadena

el mayor número están vinculados al objetivo de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible también

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible además de impulsar la optimización sostenible del transporte

promover la gestión sostenible del agua las prácticas de eficiencia energética

en los procesos de producción agrarios y la protección de la biodiversidad todas estas cuestiones

a los objetivos de desarrollo sostenible desde el sistema agroalimentario las debemos impulsar entre todos los ciudadanos las administraciones las empresas el sector público el sector privado y trabajando desde lo local para conseguir los objetivos a nivel global el gobierno vasco presentó el plan estratégico para la gastronomía y la alimentación de euskadi dos mil diecisiete dos mil veinte

un plan que desde mi modesta opinión ha sido un fruto de un buen trabajo muy próximo a los diferentes sectores y que desde un profundo

detecta las fortalezas las debilidades y aquellas tendencias hacia el futuro donde se debe trabajar un plan que quiere trabajar para lo que llama el mismo las cuatro s de la alimentación y la gastronomía vasca segura saludable singular y sostenible

desde la producción primaria hasta el consumo de alimentos pasando por la transformación la distribución la comercialización hasta llegar a la gastronomía un plan de verdad que le quiero decir señora consejera sin ánimo de halagarle sino porque me parece bueno me parece real me parece

didáctico creo que ha sido un buen trabajo y no me preocupa nada reconocerle este plan tiene tres anexos de apoyo el primero son los distintos planes estratégicos de euskadi que guardan relación con el plan estratégico de la alimentación y la gastronomía me parece importante esa relación y ese vínculo

y hay un tercer anexo que tiene las tendencias y desafíos globales según la fao y en este ámbito dice

de desarrollo sostenible se precisa un nuevo marco de gobierno y aquí hace referencia a unas consideraciones globales genéricas de gobernanza de gobierno responsable de alcanzar los objetivos es clave el trabajo de abajo hacia arriba que es preciso movilizar los recursos nacionales como las opciones unos criterios básicos

y desde este marco que nos parece importante esta herramienta esta percha yo le quiero preguntar si ustedes están pensando

para lograr el cumplimiento de los retos de los objetivos de desarrollo sostenible para la sostenibilidad del sector agroalimentario es decir cómo vamos a contribuir

conseguir los objetivos de desarrollo sostenible

porque habitualmente usted y yo solemos discutir mucho pero me alegro que en muchas ocasiones también podamos llegar a acuerdos

la estrategia la agenda de desarrollos sostenible tiene muchas aportaciones que se pueden realizar desde el ámbito de la gastronomía y la alimentación si bien es cierto que

lo estamos trabajando no solamente en el sector agroalimentario sino que participa de una serie de actuaciones de forma conjunta por tanto la gobernanza sí que estamos tratando de hacerla de forma conjunta desde todo el gobierno ahora bien

se observa que es necesario establecer una gobernanza concreta para el tema

ninguna dificultad en poner en marcha una reflexión en ese sentido en este momento qué estamos haciendo para participar en ese conjunto de actuaciones bueno pues desde el departamento y desde la viceconsejería de agricultura pesca e industrias alimentarias

acciones que pueden contribuir a cada uno de los diecisiete objetivos es así como lo estamos trabajando pero insisto

de otra manera no nos cabe duda que son estas las actuaciones que tenemos que hacer sí pero que no son las únicas y que probablemente habrá que emprender algunas más

a la pobreza en todas sus formas en el mundo bueno lo que estamos tratando de hacer es impulsar actuaciones de contribución social y laboral

garantizar condiciones de trabajo y de salario adecuadas para todos los trabajadores y trabajadoras con especial atención

un plan de acción en el que además no trabajamos únicamente como gobierno sino que incorporamos a diputaciones a sindicatos agrarios y por ejemplo a una entidad como cáritas en el segundo de los ejes el de combatir problemas asociados al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición

sostenible bueno además del plan estratégico al que usted hacía referencia estamos trabajando con prácticas de cultivo sostenible dentro

seguro que usted conoce destacando además el plan de colaboración en seguridad alimentaria con el departamento de salud otra de las actuaciones no la única

también con el departamento de salud estamos estableciendo campañas destinadas a la promoción de vida saludable de hábitos de vida saludable de hábitos de alimentación saludable fomentando

con programas e iniciativas en conjunto con el departamento o apoyando la adopción de protocolos eficientes en temas de seguridad e higiene en productos alimenticios

muy importante dentro de nuestra estrategia de alimentación o verificando el cumplimiento de todas las condiciones reguladoras en ese sentido en el cuarto de los ejes garantizar la educación inclusiva equitativa y de calidad promover oportunidades de aprendizaje para todos bueno pues tenemos que formar a diferentes agentes en la

formar en derechos humanos también para todas esas personas que van a estar atendiendo a los que acuden al trabajo temporero bueno son unas actuaciones que van en cualquier caso dirigidas a cada una de las líneas de actuación y que alguna de ellas además colabora en varios de ellos

evidentemente tenemos el estatuto de las mujeres agricultoras que recientemente comentábamos que no habíamos hecho el esfuerzo quizá suficiente para ponerlo en marcha y que es voluntad nuestra y que ya estamos en estos momentos

contribuya realmente a esa igualdad entre hombres y mujeres también en el trabajo del campo

la disponibilidad de agua y la gestión eficiente del mismo actuamos con todas las medidas dispuestas desde el pdr desde pero introducimos también nuevas tecnologías en agricultura que nos permitan utilizar

rendimiento y fomentando tecnologías diferentes que nos permitan entre todas las administraciones hacer esa gestión eficiente del agua con una participación muy clara de ura en el séptimo de los ejes que es el de garantizar el acceso a la energía

pero con proyectos asociados a la biomasa como usted conoce también sin duda que nos permiten por una parte contribuir al desarrollo de energías renovables y por otra parte además contribuir a generar o a utilizar esa biomasa que en estos momentos

tiene un doble objetivo e introducir prácticas de eficiencia energética en todas las prácticas agrarias en estos momentos

sostenido inclusivo para todos aquí sí que hay un elemento que no existía en estos momentos y que estábamos trabajando que es el plan sectorial de prevención de riesgos laborales para toda la cadena de valor alimentaria estamos trabajándolo en estos momentos y esperamos tenerlo en funcionamiento cuanto antes hasta el año dos mil veinticinco y que creemos que es un elemento también diferenciador y generador por una parte de empleo y por otra parte de mejora de esas condiciones de empleo también conoce usted los programas gaztenek itsasoratu bueno todos esos programas que nos permiten generar empleo

si hablamos de infraestructuras e industrialización sostenible y fomentar la innovación también existen programas en este momento funcionando y vamos a continuar programas europeos que nos permitan además trabajar con otras regiones europeas y que mejoren la situación a nivel un poco más internacional y no nos quedemos solo desde nuestra aportación propia ahí tanto el cluster alimentación como los centros tecnológicos tienen un papel fundamental

propias nuestras sino que trabajamos de la mano de acción exterior puesto que en todos esos programas de cooperación al desarrollo también creemos que tenemos un papel

liderados por el lehendakari se habló de trabajar en aquellos ámbitos que dentro del proceso de paz en colombia también iban a quedar

experiencias positivas yo creo que podríamos alargarnos y no quiero

en cada una de las actuaciones que es como se ha definido en este momento desde el gobierno que vamos a trabajar cada departamento en cada línea pero insisto si usted considera que podemos hacerlo

lo podremos analizar también y ver si existen actuaciones diferentes actuaciones que podamos llevar a cabo y que mejoren

diecisiete ejes pero que no voy a continuar desarrollando por eso para no alargarme en exceso y no aburrirles a ustedes esa es la forma en la que estamos trabajando desde un desarrollo

en todo el gobierno y aportando todos y cada uno de nosotros al plan de desarrollo sostenible eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

en la consecución y en la manera de trabajar vamos a coincidir porque desde luego desde el grupo popular tenemos un interés muy importante de

creernos los objetivos y creer que en toda nuestra acción tiene que estar la visión de los objetivos

porque si no pasa el tiempo y al final no llegamos a conseguir estos retos que tenemos encima

con esos treinta retos que yo le decía que este grupo de empresas ha trabajado a nivel nacional y que los ha identificado y en unos con más intensidad que en otros pero al final son los que

se aglutinan en torno a los objetivos que puede contribuir el sector agroalimentario y una parte muy importante es el reto de producción consumo responsable todo lo que es la producción la transformación

y que entendemos que la cadena de valor esa cadena que va desde el campo al plato

información sobre los objetivos de desarrollo sostenible y hay que empezar desde nuestro punto de vista por la sensibilización sobre los objetivos

y el sector privado entendemos que la empresa forma una parte importantísima en todo este proceso porque

confluyen en un porcentaje elevadísimo de empresas y que cualquier empresa además

con visión de futuro y responsable con el presente y con el futuro

y eso también lo tenemos que transmitir porque es valor añadido para ellos mismos por lo tanto que de forma integral con una adecuación de los sistemas de producción y consumo puedan

ir aplicando o desarrollando los objetivos de desarrollo sostenible

que el desarrollo sostenible también puede contribuir el consumidor un consumidor informado y consciente de lo que está haciendo porque

que el consumidor vaya adquiriendo puede cambiar muchos aspectos y eso también nos parece importante en definitiva lo que estamos hablando es que nosotros

una moción que recoja algunos elementos básicos o algunas acciones básicas que consideramos importantes

impliquemos todos de alguna manera y que toquemos esos aspectos que creo que son convenientes trabajar para que

están recogidos pero que yo creo que debemos de incidir de una manera importante y que a la hora también de pensar desde esta cámara y desde la acción política lo tengamos muy asumido y seamos muy conscientes de lo que implica cada una de las decisiones que tomamos o que proponemos y que

estén implícitos de alguna manera en nuestra acción diaria por eso agradecerle su respuesta y bueno

de alguna manera vincula a toda la actividad que en este momento o las herramientas que en este momento la administración tiene y lo vincula con una parte muy importante que es la

y como le digo todo ese ámbito que es desde el campo al plato

y en la labor de sensibilización quizá nos hemos centrado más en la sociedad en estos momentos

en todos esos centros partiendo no solamente de cómo debemos comer cuáles son los hábitos de consumo

estamos hablando de evitar desperdicios bueno existen planes en todo ese sentido campañas de sensibilización y más allá de todo esto dedicados a escolares dedicados a la sociedad en general sí hay un ámbito concreto de las empresas estoy de acuerdo con usted que quizá lo hemos desgranado en cada uno de los ejes pero que también podrían ser considerados como empresa pues desde el punto de vista de calidad de condiciones en el trabajo

de cómo se produce esa trazabilidad en el proceso de fabricación de cómo incorporar la regulación de cómo mejorar la calidad todo el cumplimiento de toda esa regulación que existe que es muy estricta en alimentación y que creemos sinceramente que tenemos que mejorar algunos de los aspectos que tenemos en estos momentos que ya se están haciendo y quizá deban ser considerados así también desde el punto de vista por ejemplo en pesca yo creo que nuestros arrantzales son precisamente algunos de los más involucrados

en el evitar la sobre pesca bueno creo que existen una serie de actuaciones sin duda mejorables pero que están dedicadas a ello y comparto con usted en que además de lo que es producción y transformación y llegada a la gastronomía y a lo que todos los días

por supuesto las empresas tienen un papel primordial y crucial y todas las instituciones junto con la sociedad y

realizamos por tanto le agradezco las aportaciones que vayan a realizar y sin duda las consideraremos eskerrik asko

azken hamar urteetan ez dugu ia aurrerapausorik eman la generación renovable en euskadi en dos mil diez

es alrededor del siete por ciento si fuéramos un estado de europa seríamos el número veinticinco en una lista de veintinueve es decir cuartos por la cola en generación renovable y estaríamos en el puesto diecinueve en consumo final renovable sin embargo nuestra responsabilidad como emisoras de gases de efecto invernadero de hecho se sitúa por encima del promedio europeo y por esto nuestra situación tiene un punto de dramática eta ez naiz hasiko

egin diren plangintzak ez gaituztela eraman posizio on batetara la estrategia para dos mil diez tenía un objetivo de doce por ciento renovable y se quedó en un siete por ciento

estamos a año y medio seguimos alrededor de un siete por ciento y la estrategia tres

energética de este gobierno tiene un objetivo de veintiuno por ciento renovable para dos mil treinta con una generación local del catorce por ciento la trayectoria no invita al optimismo

y es que está hecha sobre un supuesto con una referencia que ha cambiado por completo

en el veintisiete por ciento de renovables que se estaba proponiendo al inicio por el consejo de europa así que el reto es mucho mayor y hay algo que complica aún más las cosas el nuevo objetivo del treinta y dos por ciento renovable en dos mil treinta

es para toda europa no tiene objetivos por países y es vinculante es decir que aquellos lugares en los que se llegue a esas cifras en los que no se llegue

actuando de forma insolidaria así que no podemos quedarnos con un objetivo de generación renovable del catorce por ciento en dos mil treinta mientras europa va a intentar llegar a un treinta y dos por ciento

además de lo que comentaba de que el objetivo es genérico y que lo compartimos el treinta y dos por ciento yo sí quiero hacer referencia a lo que planteamos localmente porque

de alguna forma triple y quiero recordárselo por una parte incrementar el ahorro y la eficiencia energética porque creemos que también en ese campo tenemos mucho que hacer y que aportar a disminuir el consumo y por otra parte a mejorar la situación en cuanto a parámetros de energías renovables en segundo

de los derivados del petróleo por tanto desvincularnos de todo eso y ahí en el sector del transporte tenemos mucho que hacer y hemos empezado ya a dar pasos

eléctrico y consigamos además que actuemos no solamente desde el punto de vista de energías renovables sino desde el punto de vista de generación de menos emisiones creemos que eso también es factible si pasamos a energías renovables el objetivo planteado para el dos mil treinta es el veintiuno por ciento muy alejado de ese treinta y dos por ciento

si nos fijamos en lo que hemos hecho y cuál es nuestra trayectoria creo que el veintiuno por ciento es tremendamente ambicioso tremendamente ambicioso qué me gustaría que fuera el cuarenta sí

aportación muy interesante por qué porque tenemos que aprovechar

potencialmente renovables tenemos que buscar mejorar esa posibilidad de generación renovable que en estos momentos no tenemos y le voy a dar un dato para

en euskadi precisaríamos quinientos treinta megavatios de fotovoltaica es decir unos seiscientos cuarenta seiscientos cincuenta millónes de euros de inversión a precios de hoy ocupando cuatrocientos veinte hectáreas por ejemplo para aumentar solamente

en energías renovables luego el intentar llegar a ese veintiuno por ciento

sería impresionante el esfuerzo que habría que hacer y casi no es tan importante el inversor como las hectáreas y la cantidad que necesitaríamos y vamos a pensar que lo pudiéramos hacer en tejados en polígonos industriales como lo estamos planteando tenemos dificultades para conseguir llegar a ese veintiuno por ciento tenemos que revisar el plan que tenemos en este momento en dos años

pero desde luego hoy hasta llegar a esa revisión de los dos años

lo que recoge el plan de hacerlo cada cinco años yo en este momento no me plantearía ser mucho más ambicioso porque ese veintiuno por ciento insisto con esos datos creo
que es ya muy importante para euskadi partiendo de la situación en la que nos encontramos eskerrik asko eskerrik asko tapia

sobremanera los proyectos de vida y el buen vivir de los vascos y sobre todo las vascas porque ayer mismo

euros inferiores que los de los hombres y que además desempeñamos el setenta y ocho por ciento de los empleos parciales y claro limita también

de emancipación de las personas más jóvenes una situación a revertir si como esta semana nos decía el consejero azpiazu se intensifica la apuesta de este gobierno por el desarrollo sostenible que garantiza un crecimiento sostenible que genere oportunidades de empleo de mayor calidad irauli beharreko egoera baten aurrean jartzen gaitu honek

cheshire katua alicia en el país de las maravillas liburuan agertzen den

por el agujero le conduce a un mundo repleto de seres estrafalarios y se encuentra con ese gato sonriente que también es un poco siniestro y decide preguntarle

cuál es el camino que tiene que seguir para salir de aquí el gato le responde que depende en gran parte del sitio al que quiera llegar y alicia le responde que tampoco le importa mucho el sitio entonces el gato le responde que entonces tampoco importa mucho el camino que tomas

le vale y entonces el gato le responde muy sabiamente bueno siempre llegaras alguna parte

la cuestión señora artolazabal es tener claro dónde queremos llegar

señora kortajarena nosotros sí tenemos claro dónde queremos llegar además el análisis hacia donde queremos llegar no lo hemos hecho nosotros solo sino que lo hemos hecho con la participación

y sí queremos y sabemos a dónde queremos llegar lo que también es verdad y eso comparto con usted en materia de empleo la calidad es uno de los objetivos que aparte del cuantitativo que como bien dicen los agentes económicos parece ser que vamos a conseguirlo

sí que tenemos que seguir avanzando en el ámbito de la calidad de ese empleo que se está generando y usted también me ha oído decir y no he sido nada autocomplaciente a la hora dar datos

de que tenemos que trabajar en el ámbito de la temporalidad y en la brecha salarial

es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo adicional y creo sinceramente que estamos poniendo en marcha las iniciativas para poder eliminar y reducir

en el plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte y en coherencia con el programa marco de empleo y con el de reactivación económica y así como con la estrategia vasca de empleo dos mil veinte se contempla como primer objetivo el impulso de empleo de calidad y esto viene recogido en ese documento y es un foco específico en las personas

y en concreto también en el ámbito de la juventud como contempla este objetivo estratégico

hablamos también de la inserción laboral a través de planes locales y comarcales de empleo y partimos de planteamientos básicos compartidos señora kortajarena usted y yo creo que compartimos el diagnóstico

pero creo que con las aportaciones que en esta cámara y los acuerdos que se han alcanzado tenemos también mejoras a los documentos que ya como gobierno hemos planteado nos dotamos de herramientas que nos ayudan a conseguir esos objetivos marcados y conviene recordar que la mayoría de los acuerdos adoptados en esta cámara en relación al ámbito del empleo ya los tenemos recogidos y sí que hemos implementado y reforzado políticas con medidas concretas que le voy a pasar a relatar

al objeto de que todos los agentes relevantes del mercado de trabajo puedan conocer las tendencias y oportunidades de empleo

estrategias y planes coherentes con dichas tendencias y oportunidades también estamos incorporando dentro del trabajo prospectivo desarrollado por lanbide una línea específica vinculada con la identificación y difusión de nuevas oportunidades que puedan ser aprovechadas por la vía de la generación

se van a divulgar los efectos del envejecimiento de la población activa en términos de saldos netos de empleo en el mercado de trabajo diferenciando en sus componentes de empleo

se están trabajando y desarrollando componentes de prospectiva cualitativa que enriquezcan la información de anticipación cuantitativa y que tendrán su origen en modelos de participación activa de agentes sociales y representantes de sectores productivos y asimismo se contempla también la perspectiva cualitativa con

se está poniendo en marcha un programa específico que apoye preferentemente en comarcas y municipios de especial incidencia de desempleo proyectos piloto de generación y mejora del empleo a nivel local y comarcal con amplia participación y consenso institucional

para aprovechar las oportunidades detectadas en la labor prospectiva en este sentido el pasado doce de junio en el consejo de gobierno aprobamos una convocatoria de veintidós millónes de euros para estos planes locales que suponen una herramienta para la promoción del empleo y zonas especialmente castigadas por el desempleo

en la convocatoria que hemos aprobado para este año sí se han incorporado importantes novedades que pretendemos sirvan para llegar mejor a los objetivos que nos hemos marcado el programa es ya conocido por ustedes pero sí que también teníamos claro

deberán cumplir necesariamente con los siguientes compromisos de contratación treinta por ciento destinada a personas beneficiadas de la rgi cuarenta por ciento a mujeres quince por ciento a personas mayores de cincuenta y cinco años y esto es una modificación respecto

a las mismas por ejemplo en el programa lehen aukera también un programa bueno pero que

el atractivo por parte de las empresas para acceder a realizar esos contratos hemos realizado

de una forma más utilizada por parte de las empresas por ello

que se produce una nueva fórmula de selección de personas candidatas para impulsar y facilitar la transición del ámbito formativo al mundo laboral

y también se ha incrementado las cuantías de la subvención de los contratos con mayor duración para promover mayor calidad y estabilidad hemos ampliado la cantidad de dinero destinado a estos contratos asimismo se está definiendo en lanbide también un sistema de información de buenas prácticas y programas piloto

también estamos realizando un estudio sobre la economía de los cuidados como punto de partida necesario para establecer acciones específicas para mejorar su cualificación

empresarial y vamos a incorporar una evaluación especifica del impacto de las actuaciones desarrolladas en el plan estratégico dos mil diecisiete para ver cuáles son los colectivos que para nosotros y para usted también son importantes como personas con discapacidad personas beneficiarias de rgi o personas mayores

además hemos realizado un detallado estudio dedicado al perfilado de los perceptores que tenemos en las listas de desempleados en euskadi junto con sara de la rica y su equipo

en dos mil diecisiete tenemos que saber lo que tenemos cómo lo tenemos para poder luego implementar entonces el colectivo esta bueno el estudio se ha fortalecido en las personas desempleadas registradas en lanbide

en primer lugar la distribución de todas las personas desempleadas por los tres territorios por sexo edad

en segundo lugar se ha realizado un perfilado exhaustivo de todas las personas desempleadas en la comunidad autónoma y para ello hemos separado seis colectivos

y para cada uno de estos colectivos de estos seis colectivos se muestran los siguientes elementos su distribución en función del máximo nivel educativo alcanzado primaria o menor secundaria y superior

el tiempo que llevan desempleados variable que presentamos en tres intervalos menos de tres meses de tres a doce meses y más de doce meses

dado que observamos a los individuos repetidas veces definimos que un individuo sale a un empleo si en el periodo este desempleado y en el mes siguiente está ocupado

y su situación también por último en cuanto a las prestaciones que reciben si tienen alguna prestación ninguna contributiva asistencial o rgi además

que es un programa europeo con el objetivo de facilitar y ayudar a las personas más jóvenes a iniciar su andadura en el ámbito del empleo y estas iniciativas serán incorporadas y tal y como se ha acordado en esta cámara en el siguiente plan operativo que corresponderá al ejercicio dos mil diecinueve teniendo en cuenta las pnls referidas que son del periodo actual de sesiones como usted

analizado concienzudamente es evidente que sí que estamos cumpliendo con los acuerdos que estamos avanzando pero que todavía tenemos muchas cosas en las que trabajar y que el objetivo

que ustedes y nosotros tenemos en cuanto a la promoción del empleo es un espacio en el que nos tenemos mucho

y creo que las medidas que ya implementamos en su momento más las que hemos puesto en marcha más la evaluación haremos que en el presupuesto dos mil diecinueve

no solamente disminuyendo la cantidad sino mejorando la calidad del empleo eskerrik asko artolazabal andrea kortajarena andrea zurea da hitza

yo sí que tenemos como objetivo la mejora del empleo el empleo en este momento es una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas vascas y por tanto

las políticas que hagamos no serán suficientes y desde luego yo

que los ciudadanos no sé si nos suspenden pero sí que por lo menos nos dicen que tenemos que seguir haciendo más cosas y en ello estamos

para mejorar la empleabilidad y para ello realizamos un acuerdo con la patronal con ese objetivo desde luego nunca pensamos que iba a tener las consecuencias que ha tenido

tenga claro que nosotros vamos a intentar recuperar ese diálogo social porque creemos en él porque entendemos que es la única forma de abordar los problemas con las soluciones

de una agrupación de empresarios pero que también existen otras fórmulas empresariales que en euskadi como usted bien sabe son importantes y desde luego para nosotros también lo son no hemos puesto la política de empleo en manos confebask nunca

de seguir mejorando en el ámbito del empleo y

porque a pesar de que es verdad y así también lo reconocemos hay que trabajar en la calidad del mismo sí que se está produciendo una mejora sustancial del empleo y los datos son objetivos y ahí están se están incentivando contratos

de cumplir esa incentivación para este primer año ha sido superado con creces con el objetivo que nos habíamos planteado estamos también

en este año dos mil dieciocho prevemos que haya tres mil doscientos setenta puestos que queden cubiertos tras las jubilaciones de los titulares de plazas públicas de empleo además

siguen teniendo esas oportunidades para avanzar y tanto el programa marco de empleo y reactivación económica como el plan estratégico de empleo realiza un seguimiento y un análisis de todas las materias que tiene que ver con los colectivos afectados en el ámbito juvenil en el ámbito de la mujer en el ámbito de las personas

de dieciséis era del dieciséis por ciento mayo del dos mil dieciocho es del quince por ciento estamos haciendo las cosas y tenemos resultados que tiene que incentivarnos para seguir avanzando

dentro de lo que es el eje del plan estratégico de empleo ya venimos trabajando en estrecha colaboración con el departamento de justicia y trabajo y con el departamento de desarrollo económico y de infraestructuras porque parte de la calidad del empleo pasó por las condiciones que los trabajadores tienen y para ello es preciso hacer un análisis y una investigación de las mismas

o facilita las oportunidades que los empresarios tienen a la hora de invertir en euskadi

junto con emakunde y concluye indicándole que en estos momentos estamos realizando esa evaluación intermedia de la estrategia vasca del empleo dos mil veinte

para que sea analizado y mejorado con las aportaciones que todos los agentes tengan que hacer

oportuno para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos que aquí se han adoptado y de los objetivos que nos hemos marcado como gobierno y como sociedad para avanzar en materia de empleo mila esker

eskerrik asko mahaiburu andrea antes de comenzar mostrar

al asesinato de sofía la mujer encontrada ayer quiero también mostrar toda mi solidaridad con todas las mujeres supervivientes de violencias machistas

hoy están más solas y desprotegidas ez zaudete bakarrik dizuegu eta orain galdera egingo dut mujer sola dos criaturas superviviente de la violencia machista con una orden de alejamiento de veinte meses

vuelve con su agresor como casi el cien por ciento de los procesos de violencia se separa

resolución del ararteko y sentencia ya firme por cierto contrarias al posicionamiento de lanbide
y mientras tanto dieciséis meses sin cobrar cómo va a reparar a esta señora eskerrik asko

entendiendo desde el correcto cumplimiento de la ley en el caso por el que usted nos pregunta se producen dos incumplimientos claros y graves de la ley por parte de la persona perceptora dentro del habitual tratamiento que realiza lanbide con cada beneficiario de renta de garantía de ingresos el diecinueve de enero

que implica ser perceptor de la renta de garantía de ingresos y como consecuencia de ello firmó un convenio de inclusión que recoge dichos términos en su itinerario de inclusión omo cualquier perceptor de renta de garantía de ingresos

para realizar un seguimiento de su situación cita a la que no acudió ante este incumplimiento de su obligación

y en marzo se le suspendió cautelarmente la prestación asimismo no comunicó el cambio de su unidad convivencial ya que cambió su estado civil y tuvo un hijo sin notificarlo a lanbide como exige la ley por tanto

recogidos en la ley que motivaron la suspensión cautelar de la prestación únicamente se acercó a la oficina de lanbide cuando se produjo esa suspensión

y la condición de víctima de violencia de género que surge posteriormente nada tiene que ver con la concesión de la prestación a cualquier persona con dos incumplimientos de obligación se le aplica una extinción de un año y sin posibilidad de solicitarla de nuevo en ese tiempo

no ha puesto en marcha el procedimiento sancionador contemplado en la normativa vigente y simplemente ha aplicado el periodo de carencia recogido en la ley cuatro barra dos mil once para supuestos de extinción como el que se da en este caso en esta situación es importante destacar que el juzgado interpreta

difieren del motivo de la extinción y los cambios que se han producido en la convivencia en la unidad de convivencia es lo que provoca que se resuelva a favor de la demandante el fallo judicial

como consecuencia de un defecto de forma y no valora el fondo de la cuestión ante esta situación en aquellos casos en que una reclamación contencioso administrativa se estima por parte de los jueces

aplica el fallo de dichas sentencias procediendo a regularizar según el contenido de dicho fallo las cantidades derivadas de la misma con efectos desde la fecha que proceda en el indicado por la sentencia

puede los lleva se olvida alguno sí tiene dolor sus hijos reclaman su atención imagine que la ingresan para operarla y cuando la tienen en la mesa de operaciones le dicen que se ha olvidado usted un papel

ha perdido el derecho a que le operemos se levanta y pregunta pero por qué bueno

claramente tiene usted un año de penalización ha perdido el derecho a la salud

subjetivo reconocido por la ley esto es lo que han condenado los juzgados a lanbide sus malas prácticas y esto es violencia institucional por un momento se ha molestado lanbide en ver más allá del número de expediente sabemos de sobra que entre las obligaciones está comunicar cualquier cambio pero no se dan cuenta que esa ausencia de comunicación puede atender a una situación de vulnerabilidad

gracias a lanbide el nacimiento de un bebe comunicado con retraso

dónde queda la proporcionalidad dónde queda la excepcionalidad de las situaciones de quienes viven bajo la lacra de la violencia machista si la violencia machista no es una causa de fuerza mayor

un mensaje de que están solas de que nadie las está ayudando y de que denunciar no merece la pena y eso no nos lo podemos permitir señora artolazabal un mensaje que dice que lanbide no es una alternativa para ellas y que su derecho a la garantía de ingresos no es tal

con la violencia machista insisto qué van a hacer para reparar estos dieciséis meses de supervivencia sin ingresos económicos cuánto va a tener que esperar esta mujer no vale criticar la sentencia de la manada y reproducir decisiones señora artolazabal

no podemos contar con las instituciones para romper con la violencia porque las instituciones también son

y por favor no me repita que la ley es para todas igual porque hasta una estudiante de primero de trabajo social conoce el principio de equidad y las políticas de acción positiva y sabe que tratar igual situaciones desiguales es la mayor de las injusticias

y no quiso explíqueme también por favor por qué explíqueme por qué la cerrazón de lanbide este lunes se lo dijeron en la calle a usted

de mirar a otro lado pongamos a las mujeres en el centro besterik ez mila esker eskerrik asko guanche andrea artolazabal andrea zurea da hitza

presidente andrea yo señora guanche ya es la segunda vez que venimos con un caso similar a este parlamento y además me parece que usted

un caso que desde luego a mí también me provoca una situación incómoda pero que además estas personas que

tienen una serie de obligaciones que cumplir si usted lo que me está diciendo es que las personas perceptoras de rgi están exentas del cumplimiento de la ley

los que vamos a hacer esa lectura lo que sí que es claro y es evidente es que había una cita a la que esta persona podía haber acudido porque su orientadora estaba preocupada por su itinerario de inserción y de empleabilidad y no acudió

y faltó a la cita porque no sabemos exactamente por qué porque ella lo que reconoce es que se

acudir ella reconoce que se le olvidó acudir yo no soy responsable de lo que hacen los

los que tienen los derechos y también tienen las obligaciones señora guanche lo que sí le quiero decir
es que estas personas están protegidas por un sistema que desde luego eskerrik asko

gracias señora presidenta señor consejero decía la prensa el martes doce de junio después de nueve días los efectos de las fuertes trombas de agua registradas el tres de junio en bizkaia y el norte de álava

una semana después once playas afectadas por contaminación fecal y nadie ha dado una explicación de cuál es la causa

de salud desaconseja el baño el baño puede prestar un riesgo para la salud decían

en niveles muy superiores a los permitidos algo falló en este aviso porque se permitieron cursos para niños de surf y kayak en los primeros días de estos hechos

a aliviar de líquido a la depuradora de galindo para evitar que el sistema se desbordara ese caudal se sumó al que ya llevaban los ríos

y los ciudadanos se preguntaban qué pasa no ha habido respuesta cuánto va a durar según el tiempo fuerte si hay fuerte viento o fuerte oleaje se limpiará antes

gracias señora presidenta señora ocariz nos pregunta por dos motivos por los que se ha generado

quitado una parte de mi trabajo en esta tribuna porque

en otras ocasiones la contaminación registrada tiene su causa en los puntos de alivio de los sistemas de saneamiento destinados a evacuar el exceso de caudal originado

de este mes nuestra red de saneamiento son mayoritariamente unitarias y en circunstancias normales

pero cuando hay precipitaciones a las aguas residuales se une todo el caudal

y si las precipitaciones son especialmente intensas como fue el caso en varias jornadas

de forma que disponen de puntos de desbordamientos o aliviaderos por los que

en las actualizaciones de vertidos de las confederaciones hidrográficas y se contemplan también en la directiva europea de dos mil seis calidad de agua de baño y así esta directiva se define como contaminación de corta duración

por causas que sean claramente identificables y que no se prolonguen normalmente

desde su detección y este es el caso que ha ocurrido en las playas vizcaínas al que hacía usted referencia donde hubo que prohibir el baño o

las personas por la presencia de bacterias propias de las aguas fecales

señor consejero setenta y dos horas no doce días

la causa de estas situaciones señor consejero ereaga y arrigunaga las dos únicas playas de bizkaia donde

distintivo de calidad que durante doce días ha compartido espacio

fecal por colapso de las redes de saneamiento señor consejero

altamente deficitarios y peligrosos para la salud señor consejero pero estos hechos no son una novedad señor consejero

no hace controles del agua salud por lo tanto

y todos los veranos hay contaminación fecal por ejemplo en septiembre de dos mil diecisiete estuvieron cuatro días no setenta y dos horas y el departamento de salud comunicó que había detectado índices elevados de contaminación fecal también en esta zona de playas con ereaga y el entorno

los vecinos se preguntan y nadie les ha contestado cómo es posible que

europeos de calidad y ahora estén con la bandera por contaminación fecal

cómo es posible que tengamos el martillo pilón de ura exigiendo en álava un gran consorcio único para la gestión del agua como el mantra que lo cuida todo y lo protege todo cuando bizkaia tiene un consorcio

de buena gestión señor consejero sí es garantía de ocultismo de no respuesta de no transparencia

y señor consejero además de lo expuesto tiene alguna cuestión algo que ver en todo esto las obras de vaciado del canal de deusto para convertir zorrozaurre en isla

y las características de esos movimientos y de los lodos eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko

sistema de conducciones de depuración

yo le respondo y le digo lo que ha ocurrido entiendo que en esta ocasión como en otras ocasiones

y se ha hecho una recomendación por parte del departamento de salud para que

se analiza permanentemente la situación y se va comunicando a la ciudadanía en función de la evolución de esos análisis por lo tanto

en las situaciones que ha habido de precipitaciones a principios

no hay sistema que pueda aguantar sin que se produzcan alivios no hay sistema que pueda aguantar sin que se produzcan alivios y eso lo que tiene que hacer es

y de hecho existe un protocolo de comunicación entre el consorcio de aguas de bilbao bizkaia la dirección de salud y el gobierno vasco

lógicamente este protocolo ha funcionado se está también trabajando en un nuevo protocolo con el consorcio de aguas de busturialdea que

de saneamiento de este ámbito puedan desarrollarse en la medida que se están desarrollando con los plazos previstos lógicamente hay actuaciones que se están acometiendo y que van a acometer habrá que hacer más parques de tormentas como el que se está construyendo en galindo

etcétera pero señora lópez de ocariz cuando llega una situación

de este mes es imposible que el sistema aguante solamente en el sistema galindo lamiako se han evacuado ciento once mil doscientos veintiuno metros cúbicos

desde euskal herria bildu hemos seguido la senda que marcamos con los retos que definimos para el dos mil dieciocho y para el futuro del país retos que observamos que diferentes encuestas muestran que están entre las principales preocupaciones de la sociedad vasca desempleo condiciones laborales dignas

en euskal herria bildu nos preocupamos por las llamadas cosas de comer por el día a día de las personas y seguiremos en ello no le quepa duda

porque es nuestro deber y porque es nuestro compromiso con la ciudadanía ustedes han definido cuatro grandes retos a los que deberán enfrentarse en los presupuestos del dos mil diecinueve retos de envergadura muchos de ellos alineados con los que ya para dos mil dieciocho

un camino para hacer de este un país mejor envejecimiento de la sociedad pobreza necesidad de vivienda conciliación emancipación educación

transporte sostenible y eficiente y gestión sostenible y pública del agua son algunas de las cuestiones a abordar sin demora alguna son muchas de estas cuestiones las que desde euskal herria bildu hemos traído a esta cámara en busca de acuerdos de país

también hemos conseguido lograr son retos señor consejero ante los que se requiere liderazgo político y una actitud proactiva por parte de todos retos que requieren pasos firmes visión de país y un rumbo claro retos ante los que este gobierno deberá definirse herri ikuspuntua lidergoa

ahora seguramente a esta música habría que ponerle alguna letra para ver si somos capaces de cantarla juntos pero bueno esto

aprobó las directrices presupuestarias del presupuesto del dos mil diecinueve se puede decir que hemos dado el pistoletazo de salida para la elaboración del presupuesto del año que viene

a los resultados para afrontar de forma eficaz y eficiente los cuatro retos como decía que tiene el país la demografía

la digitalización y la internacionalización estará marcado por el alineamiento del programa de gobierno con la agenda dos mil treinta de naciones unidas tal y como queda recogido en la agenda basque country dos mil treinta

que garantice los servicios esenciales a todas las personas y un crecimiento sostenible que genere oportunidades de empleo de mayor calidad

de mundo centrada en la persona jarraibide horiek lau erronka dituzten aurrean demografiaren erronka

la senda de presupuestos estratégicos este año se pretende ahondar en la orientación a resultados

de que no solo se va a hacer correctamente lo que hay que hacer sino que vamos a hacer lo correcto a esto hay que añadir el paso firme hacia la igualdad ya que por primera vez se establecen las normas técnicas y creo que es algo importante

dentro de los objetivos principales de todos y cada uno de los departamentos

y el futuro de euskadi esta misma semana he tenido la oportunidad de participar en un curso de verano organizado por el eustat

demográfica y por ello nos implicaremos en las políticas

políticas que incluyen actuaciones como reforzar el modelo

facilitar la realización de proyectos vitales de personas en las mejores condiciones posibles mejorar la adecuación de la renta de garantía de ingresos a las familias con hijos de manera

una política de vivienda que facilite el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos y ciudadanas de euskadi mejorar el acceso de los padres a los servicios de guardería favorecer la emancipación de la juventud y un largo etcétera en cuanto al reto de la educación

como la mejor inversión que una sociedad puede hacer

dependen en gran parte de la educación resulta clave que la educación sea de excelencia universal e inclusiva

y creencias así como los derechos humanos y la defensa de la diversidad una educación que reúna todos estos atributos es una inversión en cohesión social y sostenibilidad euskadi no puede permitir el lujo de prescindir de los jóvenes de hoy que serán los mayores de mañana

y el bienestar futuro del mismo modo la investigación científica de excelencia es un vector de desarrollo económico que toda sociedad avanzada debe cultivar y desarrollar a través de las universidades los grupos de investigación y de los centros de excelencia la digitalización

como guía para lograr economías de escala que apuesten por las fortalezas de euskadi necesitamos que refuercen su posicionamiento global

y lugar en el mundo que ofrece respuestas locales a los retos que son globales se trata de seguir avanzando en la innovación científica y tecnológica afrontar la cuarta revolución industrial a través del plan de industrialización y apoyar la transformación

la internacionalización por su parte se encuentra estrechamente relacionada

la inversión pública en infraestructuras la innovación con el compromiso como examen de crecer un cinco por ciento anual

adicionalmente se apuesta por abordar la complejidad

a través de energías renovables de la evolución hacia un modelo de transporte limpio sostenible y eficiente y la vertebración de euskadi

vinculado dicho análisis con la elaboración de un marco económico presupuestario plurianual que complementará las presentes directrices se realizará dentro de un horizonte como decía plurianual que transcienda a la legislatura

en los que es preciso ahondar y continuar con el camino emprendido y estoy seguro y además usted lo ha manifestado o eso es lo que al menos lo que yo le he interpretado señora pinedo

que desde el gobierno en estos ámbitos estamos planteando esan duzun bidea nik uste dut

me preguntaba también cosas puntuales en tema de cohesiones de la yo sinceramente prefiero

que no nos corresponde y además creo sinceramente que no debo hacerlo lo que supuestamente el gobierno central podría perdonar condonar como estaba diciendo en los términos de deuda que tienen las comunidades autónomas

resolvimos los nuestros tenemos una ley quinquenal para cinco años perfectamente aprobada

y la relación institucional con el gobierno central funciona con toda la normalidad eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna pinedo andrea zurea da hitza

azpiazu ha empezado usted con buen pie

me hablaba de la música y de la letra y yo hoy he escuchado mucha música

espero poder escucharla y sabe usted que le escucharé atentamente

pero no ha pasado usted de la música hoy le he dicho y se lo he dicho en mi primera intervención que esta vez hayan ustedes marcado cuatro retos que es un poco también en la línea de lo que

a la consejera de vamos a marcar un camino vamos a intentar definir un camino

cuatro retos muy importantes y como yo le he dicho que en cierta manera están alineados con los retos que desde eh bildu ya le veníamos marcando desde ejercicios anteriores pero lo importante no es solo que tengamos los retos lo importante es qué esfuerzo económico vamos a hacer para llevar adelante esos retos para hacer frente a esos retos esos retos que la sociedad vasca está reclamando en la calle

empleo pensiones políticas sociales educación fundamental para el futuro de este país

lo que yo le vengo a decir es que necesitamos nuevos equilibrios en los presupuestos

que tiene la sociedad vasca eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos para el ejercicio dos mil diecinueve y yo hoy lo que quería saber era

cómo iban a alimentar esos retos porque eta zuk

askotan esan dut el principal objetivo de las políticas públicas es el bienestar de la sociedad a la que sirven

y hoy usted me ha dicho muchas cuestiones en relación al reto demográfico al reto educativo y demás

son cuestiones fundamentales pero el problema es qué pasa con los recortes por ejemplo que existen en las políticas de pobreza

hoy por hoy recortes en política de pobreza existen recortes en políticas sociales que están algunos demasiado tiempo atrás demasiado tiempo atrás y todo eso necesita y requiere una respuesta firme de este gobierno y cuando yo le hablo de firmeza de liderazgo y de tener un rumbo claro sabe usted que esto no son cosas nuevas

porque creo que es la manera de hacer política desde un gobierno tener un rumbo claro un liderazgo y no dejar que otros te marquen el camino porque tú como gobierno

eso sí por todos aquellos que quieran hacer el camino contigo pero hori da garrantzitsuena esan dizudana eta nik gauza bat bakarrik bukatzeko

me ha dicho que solo ha oído música que no ha habido letra yo creo que para una primera vez

estoy convencido además de que la buena marcha de la economía nos va a permitir diseñar un presupuesto a la altura de las necesidades de verdad sabe usted que hemos revisado al alza nuestras previsiones de crecimiento económico recientemente y planteamos para el año dos mil dieciocho un crecimiento del pib del dos coma ocho

dos coma tres para el año dos mil diecinueve esperemos que para el año que viene vaya a ver cierta ralentización en cuanto al empleo estas previsiones nos dan que se crearan este año dos mil dieciocho diecisiete mil ochocientos empleos ochocientos más de los que pensábamos en las previsiones anteriores

y que la tasa de paro se situará por debajo del diez por ciento en la segunda mitad del año dos mil diecinueve por lo que se cumplirá uno de los objetivos estratégicos

no quiere decir que nos vamos a parar aquí cumplimos un objetivo y seguimos trabajando en favor de la creación de empleo estos datos son efectivamente positivos entendemos para euskadi

para hacer cosas sabemos que en la micro todavía hay problemas considerables muchos de ellos derivados de la reciente crisis económica y lo reconozco precariedad lo hemos dicho en muchas ocasiones paro todavía importante

que el riesgo de pobreza en euskadi es del ocho por ciento cuando la media de españa por ejemplo es del veintiuno y en andalucía o en extremadura es el treinta y cuatro no no yo no quiero decir que haya aquí un riesgo de pobreza hay un riesgo de pobreza que es la tercera parte

y la cuarta parte por ejemplo que en andalucía o en extremadura yo creo que ese es un dato positivo

también es positivo entonces lo positivo también pongámonos en la mesa y que haya menos fraude

llevar adelante las políticas públicas seguiremos en todo caso reforzando las políticas sociales para corregir estos desequilibrios

del gobierno por otro lado hemos de ser conscientes y no podemos olvidar aunque nos guste más o menos que debemos cumplir con las reglas de estabilidad

que europa nos obliga a esta cuestión que conseguiremos seguramente recursos estructurales que nos permitan aumentar el gasto por encima de la regla de gasto de eso podemos hablar también

unos buenos presupuestos que atiendan a las necesidades de las personas y que impulsen la actividad económica y el empleo

me pregunto si los partido políticos aquí representados vamos a ser capaces de aprovechar la coyuntura

a cubrir las necesidades de los cuatro retos a los que me he referido quiero aprovechar ya lo he hecho creo pero quiero aprovechar esta oportunidad que usted me brinda hoy

políticos y los grupos parlamentarios presentes hoy aquí vamos a enfocar

y posteriores o vamos a andar mirando para atrás vamos a centrar nuestra mirada en la estabilidad y en las políticas y en las personas o vamos a dejar

de nuestro entorno por parte del gobierno yo creo que lo tenemos claro apostamos por garantizar la estabilidad

la sociedad vasca creo que se lo merece después de pasar una crisis económica

que permitir desde la política somos responsables de que este país tenga un presupuesto capaz de resolver con realismo las necesidades que existen en nuestra sociedad

comprometernos el gobierno vasco lo está plenamente es nuestra responsabilidad pero también creo que es responsabilidad de este parlamento

en el plan de salud de su departamento dos mil trece dos mil veinte el objetivo cinco punto seis es el de garantizar la calidad del entorno ambiental

a través por un lado del control y seguimiento de los riesgos medioambientales y por otro lado a través de la información a la ciudadanía nuestro grupo considera que a día de hoy es necesario implantar nuevos protocolos de actuación porque ni se está

erantzukizuna zuena da ardura la responsabilidad de garantizar la calidad del aire en euskadi es del departamento de sanidad no es del departamento de medioambiente medioambiente mide la contaminación

y es responsabilidad de sanidad garantizar esa calidad del aire es mejor prevenir que curar usted lo sabe mejor que yo y además usted sabe porque los datos de las organización mundial de la salud están ahí que la polución mata a más de siete mil personas al año en españa por lo tanto suponemos que a euskadi

sin embargo ante esta situación lo que tenemos es que el último informe de ecologistas en acción dice que en euskadi superamos

que en otros contaminantes no estamos haciendo mediciones y que además estamos reduciendo el número de estaciones de medida de la red de calidad del aire

a su disposición en principio tiene múltiples deficiencias múltiples deficiencias por un lado yo voy a intentar explicárselas de una forma más o menos didáctica y amable y voy a utilizar

por un lado le voy a decir la red de calidad del aire establece los valores legales de contaminación pero no los valores de la organización mundial de la salud mire estos son unos picos registrados en durango

en verde le he puesto cuales son los límites que marca la organización mundial de la salud

son los límites legales el departamento de medio ambiente a lo sumo bueno no les avisa pero a lo sumo de avisarles les va a avisar cuando pasen

sin embargo la organización mundial de la salud dice que ya hay riesgo a partir del límite verde pero ustedes no tienen la oportunidad de enterarse de esto no tienen la oportunidad de enterarse esto

importante porque a usted los límites que le importan son los de la organización mundial de la salud no los límites legales que también pero además la red de calidad del aire a veces no mide y a veces mide mal hay fallos en las cabinas hay datos invalidados

hay meses completos de datos invalidados no sé sabe muy bien por qué y a veces

pero los resultados no se ven fíjese esta es otra gráfica también de durango

otero de eh bildu empieza a subir la contaminación y curiosamente cuando llega a los límites más altos de contaminación

desaparece la señal y vuelve a aparecer cuando ha bajado desde la red de calidad del aire más de una vez han dicho que esto se debe a que hay que validar los datos que la validación automática tarda una hora

hacen esa validación en los casos en los que sube mucho la contaminación hacen esa validación manual un mes han tardado en hacer

si usted quiere saber los resultados de la cabina de durango no puede saberlo y si lo quieres saber la ciudadanía tampoco puede saberlo

se establecen en valores medios muchas veces anuales por ejemplo el benceno que se mide

establece que los límites son de cinco microgramos metro cúbico

en valor anual bien eso puede dar respuesta a una exposición crónica como usted sabe pero no a una exposición aguda en el entorno de petronor

a alcanzar picos de ciento treinta y siete miligramos en junio de dos mil diecisiete hace un año ochenta y dos

es decir multiplicado por varias veces el límite de la exposición crónica y a ustedes les interesa tanto la exposición crónica como la exposición aguda

medias que muchas veces son horarias o diarias o anuales pero además suceden cosas extrañas como que se reubiquen cabinas

justo en los sitios por donde no va a ir la contaminación o que se quiten cabinas y le voy a poner el ejemplo por ejemplo

es una zona que ha sufrido múltiples episodios de olores químicos

hasta el punto de que en el año dos mil nueve se constituyó una mesa de olores en la que participaban también las asociaciones vecinales esto fue en el dos mil nueve en el dos mil once el problema desapareció y en parte desapareció porque se quitaron las cabinas tanto de zorroza como de san ignacio la cabina más cercana ahora mismo está en barakaldo en un sentido

evidentemente la conclusión del gobierno ha sido que ya no hay problemas de contaminación en zorroza y san ignacio que ya no hay problemas y lo dicen por escrito

compuestos orgánicos volátiles en munoa barakaldo y en la estación de mazarredo bilbao y se quedan tan tranquilos

y las vecinas siguen quejándose hay otros sitios muchos sitios en güeñes en elorrio donde directamente no hay cabina

para poner las estaciones móviles el único requisito es que haya enchufe y entonces se habla con los ayuntamientos y no se pone en el sitio más adecuado se pone en el sitio donde hay enchufe y a veces incluso en el sitio donde hay enchufe pues puede suceder que no da la contaminación o incluso da la contaminación

le voy a enseñar una foto muy curiosa porque se sacó en güeñes hace año y medio aproximadamente esta es la estación móvil

porque esta estación hizo una campaña de medición que no dio nada eso dijo la viceconsejera de medio ambiente no ha dado nada está todo bien

la estación móvil que los vecinos pusieron socorro

tóxico que tenía esta estación móvil y no dio nada no dio nada con esto obviamente no le estoy haciendo a usted responsable de esta cuestión

que usted está utilizando los datos de esta red para evaluar los riesgos sanitarios de la población

que la calidad del aire sea la adecuada que la salud ciudadana sea la adecuada y a día de hoy no tienen ustedes ni capacidad de decidir ni qué se mide ni cómo se mide

es muy importante es muy importante porque si ustedes no tienen el control de esto no pueden hacer una buena evaluación de riesgos no pueden hacer una buena evaluación de riesgos y la buena evaluación de riesgos

y por el otro lado quita dudas a la población a día de hoy tenemos un problema en las calles de euskadi en güeñes ha habido manifestaciones de dos mil personas por la calidad del aire en durango se han recogido dos mil quinientos firmas en zorroza y san ignacio se tuvo que constituir la mesa de olores

en elorrio tienen un problema enorme hasta el punto que se está planteando el propio vecindario comprara su propio medidor porque no se están fiando

en conclusión tenemos una red que no funciona bien y que no cubre todos los riesgos y evidentemente usted tiene algo que decir en esta materia

para garantizar la salud de todas las personas en euskadi para ello son muchas las medidas que están puestas en marcha muchos los programas implantados así como las políticas

el plan de salud dos mil trece dos mil veinte constituye para nosotros el documento guía de todas ellas es la herramienta fundamental para fortalecer el sistema sanitario de euskadi

así como superar las desigualdades de salud existentes para ello partimos de una premisa fundamental

al tiempo que es también una responsabilidad de todos y todas de este modo el plan de salud parte de la necesidad de incorporar la salud en todas las políticas y combinar las actuaciones sanitarias e individuales en las que se centra principalmente

con las actuaciones poblacionales dirigidas a modificar

de las causas de la salud y la enfermedad y en este ámbito las condiciones medio ambientales juegan un papel muy relevante como usted ha dicho y yo coincido la contaminación atmosférica puede tener un impacto en la salud de las personas particularmente en áreas urbanas e industriales somos plenamente conscientes de ello

con acciones específicas en el ámbito medioambiental que usted ha mencionado y que llevamos a cabo en coordinación con el departamento de medio ambiente planificación territorial

que es el departamento competente en la vigilancia y control de la calidad del aire osasun planak osasuna politika guztietan ikuspegitik

jasotzen ditu en el caso de emisiones como consecuencia de accidentes o incidentes el órgano competente sería el departamento de seguridad y en nuestro caso el departamento de salud es el responsable como usted también ha mencionado de velar por la salud de las personas pero respondiendo a su pregunta

permítame corregirle el departamento de salud no es el órgano competente para implantar protocolos de actuación ante episodios de contaminación atmosférica las competencias de vigilancia y control de la calidad del aire

planificación territorial y vivienda en cualquier caso

y por ello trabajamos de manera coordinada desde el enfoque intersectorial

eusko jaurlaritzak en este sentido la política ambiental del gobierno vasco está comprometida firmemente en el logro de una sociedad con bajas emisiones de carbono con una economía verde y circular y con ecosistemas

las bases del bienestar de la ciudadanía en coherencia con la estrategia de salud en todas las políticas la unión europea ha desarrollado un marco legislativo basado en la directiva de dos mil ocho barra cincuenta cee de veintiuno de mayo

su primer objetivo es definir y establecer objetivos de calidad del aire ambiente para evitar prevenir o reducir

esta legislación como usted conoce ha sido traspuesta a la normativa estatal en estas normas se establecen unos valores límites para los diferentes contaminantes

dichos límites se establecen para promedios horarios diarios o anuales según si los efectos principales del contaminante sobre la salud son agudos o crónicos además regula las actuaciones a realizar en caso de superación de estos límites en el caso de euskadi como usted también bien ha dicho para vigilar y controlar la calidad del aire

cuenta con la red de control de calidad del aire que mide los contaminantes establecidos en la legislación todos los contaminantes establecidos en la legislación

en zonas naturales áreas urbanas y entornos industriales

a quien le corresponde realizar un diagnóstico de las causas y fuentes y establecer

con objeto de ofrecer una visión global del estado ambiental se publica periódicamente el perfil ambiental del euskadi y los informes anuales de calidad del aire

que se han reducido en gran medida los tradicionalmente altos niveles de contaminación gracias fundamentalmente a la reconversión del tejido productivo vasco

atmosférica así si bien coincido plenamente con usted en el impacto que la contaminación atmosférica puede tener en la salud de las personas supongo que usted también

en que la situación actual de euskadi en relación a la contaminación atmosférica es buena de hecho

y es mejor a día de hoy que la de otros países de la unión europea donde se supera sistemáticamente los límites de calidad del aire no obstante

se está trabajando para mejorar la calidad del aire en mayor medida que la transposición de la directriz de la unión europea y en mayor medida que la legislación actual y estamos en la línea de perseguir cumplir las recomendaciones

a día de hoy son recomendaciones y por si no lo sabe se lo digo yo recoge el actual programa de gobierno del gobierno partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi así la participación del departamento de salud

incluye varias actuaciones en las que voy a aprovechar para destacar las siguientes recabar la información para confirmar que la calidad del aire supere los umbrales previstos colaborar en la caracterización de la situación a través de la realización de analíticas en

la afección sanitaria a través del servicio de vigilancia epidemiológica interpretar los datos de calidad del aire y aplicar metodologías específicas de evaluación de riesgos como se ha realizado recientemente en el caso de muskiz

establecer conjuntamente con medio ambiente las medidas o recomendaciones para la gestión de riesgo con respecto a la salud de la población neurri guzti

en este como en otros campos siempre se puede estar mejor pero es muy importante además de conocer aquellos momentos puntuales donde en algunas áreas se superan los niveles qué medidas se toman cuando se superan conocer que no hay ningún país de la unión europea que en todas sus zonas

definidos y sobre todo ver cuál es la tendencia y la tendencia de la contaminación atmosférica en euskadi y la tendencia de la calidad del aire en euskadi si nos olvidamos de la discusión política

que es notablemente mejor va cada vez mejor y la calidad del aire es más que aceptable buena eskerrik asko

que estamos progresando en el tema de calidad de aire obviamente pero si siguiéramos

y me atrevería a decir que en los últimos años estamos viendo una regresión porque sí es cierto lo que usted dice que ha habido una mejora respecto a los años ochenta como no podía ser de otra manera es que en los años setenta la gente se moría en el momento ahora se muere en diferido entonces se moría en el momento pero es insuficiente y esto no es un debate político

no es un problema que esté trayendo yo aquí porque tengo ese capricho cuando en gueñes todos los grupos políticos se ponen detrás de una pancarta y salen dos mil personas en un pueblo como gueñes

hay un problema entonces y es un problema además que constata ecologistas en acción que dice en su informe de dos mil diecisiete no en el de los años ochenta que dice

uno coma cuatro millónes de habitantes de euskadi respiran un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la oms que como usted dice lo estamos intentando conseguir pero no lo hemos conseguido todavía

y dice siendo ochocientos setenta mil los vascos que viven en la única zona que supera un límite legal que es el bajo nervión tenemos gente que está respirando

y ante esto tenemos que evidentemente buena parte de las competencias eso no se lo voy a negar corresponden al departamento de medio ambiente

pero no la de implantar protocolos para la protección de la salud esos le corresponderán al departamento de sanidad

y tiene que buscar la manera de que ambos protocolos se hablen

porque solo tenemos a día de hoy un protocolo elaborado por medio ambiente que es para el ozono

no hay para nada más es importante lo que ha dicho usted de que estamos en la vía de cumplir pero no cumplimos los criterios de la organización mundial de la salud yo le vuelvo a sacar

y le digo que entre esta línea y esta línea hay un quince por ciento más de mortalidad lo dice la oms

un quince por ciento más de mortalidad por lo tanto importancia sí tiene cumplir los criterios de la oms rebajar un quince por ciento la mortalidad por causas de contaminación atmosférica es un objetivo

con el discurso de estamos muy bien qué hace medio ambiente cuando como usted ha dicho tiene que analizar cuáles son las fuentes de la contaminación mire en el caso de zorroza y san ignacio hay varios focos de contaminación pero hay uno que preocupaba especialmente

a parte de constituir la mesa de olores se estableció

en esa empresa una tecnología para darle más fuerza al penacho de humo entonces qué ha sucedido que el penacho de humo ya no cae en zorroza

y en san ignacio tampoco según el departamento de medio ambiente pero la contaminación está ahí

que muchas veces medimos las partículas pero no medimos qué compuesto químico llevan esas partículas y entonces a día de hoy tenemos que

de ese polvo que caía encima de la estación móvil porque es cancerígeno que

están pidiendo que se analicen su propio departamento su propio departamento está pidiendo

un montón de compuestos químicos orgánicos volátiles hidrocarburos policíclicos

solo mide tres es decir no tenemos la red de calidad del aire que necesitaríamos para garantizar la salud de la ciudadanía y por eso es muy importante es muy importante que la implicación de su departamento sea mayor no le estoy achacando a usted la responsabilidad no le estoy achacando la responsabilidad en exclusiva pero sí digo sí digo que la postura la postura

a día de hoy no es suficiente para toda esta ciudadanía que se está manifestando en las calles por una mejor calidad del aire eskerrik asko becerra jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

carezcamos de áreas de mejora y que todo esté bien solo faltaría coincido con usted estamos hablando de un tema francamente complejo donde probablemente donde probablemente

de que en este momento comparativamente con nuestro entorno

estamos aceptablemente bien y que sobre todo la tendencia es muy buena y que el compromiso del gobierno no es de cumplir

europea si no es de cumplir las recomendaciones de la organización mundial de la salud recomendaciones que igual usted no puede ilustrar no va a tener un tercer turno pero en la puerta estoy dispuesto creo yo no cumple ningún país de la unión europea ustedes participan en algún gobierno también del estado me gustaría saber

recogen ustedes lo que parece que nos está exigiendo usted aquí hoy a nosotros probablemente no y seguramente no es achacable eso al señor becerra el aire ha sido uno de los elementos medio ambientales más afectado históricamente por el pasado industrial del país vasco y sus potenciales afecciones a la salud

que es de agradecer y que es de agradecer cuando la gente

tiene una preocupación para nosotros es una fuente de interés

como desde el de salud vamos a empezar a dar respuesta como he explicado

considera la contaminación atmosférica uno de los elementos más

los valores límites legales de pm diez y pm dos coma cinco son respectivamente de cuarenta y veinticinco microgramos

y los valores de referencia de la oms son respectivamente veinte y diez en el caso del primero la mitad y en el caso del segundo bastante menos

no hay población expuesta por encima del límite legal y en torno al noventa y siete por ciento de la población en el valor pm diez estaría por debajo del nivel de referencia de la oms en cuanto al valor pm dos coma cinco el valor promedio en euskadi

y por lo tanto bastante lejos del límite legal y vuelvo a insistir considerando esta buena evolución la situación de la calidad del aire

somos conscientes de que supone un beneficio para la salud los departamentos competentes en esta materia vamos a seguir trabajando toda la legislatura para mejorar la calidad del aire en este sentido me gustaría también decir que la dirección de salud pública lleva años trabajando en proyectos en relación con la calidad del aire y la salud dos proyectos europeos y el que han estudiado la relación entre la calidad del aire y la mortalidad

que pretende establecer las relaciones entre los factores socioeconómicos los factores ambientales y los datos de mortalidad también

que ha concretado actuaciones conjuntas para mejorar la calidad de los datos de la red de control de aire de euskadi se han realizado evaluaciones de riesgo en salud asociadas a la calidad del aire en diferentes poblaciones

muchos compuestos y esperemos ver cómo se van analizando más de esos que usted ha señalado aquí especialmente aquellos que tienen límites en la legislación

que a día de hoy tenemos una de las esperanzas de vida más altas de la unión europea y más altas

generales en la resolución de conflictos se suelen aplicar las denominadas tres erres reconocimiento reparación y garantías

que se pueden aplicar en este tema si se quiere dar solución al tema de las ope bat aitortza arazo bat dagoela

los principales interesados en que esta ope finalice con todas las garantías y sabe también que hemos adoptado las medidas necesarias y seguiremos haciéndolo en el futuro y lo haremos con total transparencia y en consonancia con los puntos acordados ayer en esta cámara además creo que lo había hablado personalmente con usted antes del día de ayer con usted y con su grupo me está pidiendo cuáles son las medidas que vamos a aportar no se preocupe me tendrá que dar un poco de tiempo yo estoy convencido

tenía las suficientes medidas para garantizar y que si ha habido algún problema

individuales de todos modos no se preocupe que vamos a tener tiempo de verlo y comprobarlo eskerrik asko darpón jauna ubera anderea zurea da hitza no me ha contestado

ni aspiraba ni aspiro a pasar a ninguna historia aspiro a trabajar cada día por un sistema público de calidad a que mi sucesor o sucesora y los ciudadanos y ciudadanas de este país encuentren un servicio mejor que el que yo encontré en esa referencia trabajo todos los días

diferentes que otras y yo desde mi equivocación estaba y sigo firmemente convencido de que deberían haber sido suficientes garantías

porque es que antes de la oferta pública de empleo nadie dijo nada de nada cuando las bases por las que se organizó y celebró

incluso aquellos sindicatos que no quisieron pactar las bases pero tampoco hablaron de ninguna medida adicional ahora las critican y esta ope tuvo firma sindical la firmaron sindicato médico de euskadi la firmó satse

y estoy convencido que sin ninguna duda porque estaban convencidos y probablemente seguirán

no obstante de todos los procesos se aprende de este

va a salir más reforzado y evidentemente que vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido con el ánimo de mejorar y con el ánimo de que no vuelva a ocurrir ni siquiera la duda

dira epe hau berme guztiekin dadin hartutako neurriak garrantzitsuenak laburtuko ditut esta ope ha sido acordada con los sindicatos por primera vez ha tenido tribunales paritarios es la oferta pública de empleo en que menos jefaturas de servicio de sección

es la primera vez que el ivap ha elaborado todas las primeras pruebas de todas las categorías de las ochenta y seis categorías ha tenido un exhaustivo protocolo de seguridad para la custodia fotocopia y entrega de los exámenes todas las primeras pruebas corrección de primeras pruebas

que garantiza la objetividad del proceso como puede ver

nuevas medidas adoptadas con el único fin de que la ope se desarrolle con las mayores garantías que se elija a los mejores candidatos en igualdad de condiciones

gracias señora presidenta eskerrik asko bueno señor consejero le preguntamos hace dos semanas en relación a la

en relación a esta ope tuvimos ayer un debate

apoyado casi en su integridad por los partidos que apoyan al gobierno

sí tengo que decirle señor consejero que me han sorprendido que a este grupo le han sorprendido unas declaraciones realizadas por usted que

cuando trató de minimizar las posibles filtraciones

la pregunta es muy concreta señor consejero qué criterios le han llevado a hacer esta afirmación cuando usted además sabe que algunas pruebas han sido suspendidas y obviamente también los sindicatos han puesto sobre la mesa sospechas sobre la existencia de posibles irregularidades

minimiza las irregularidades que puedan estar existiendo

sin perjuicio además de que hay una investigación abierta y que no sabemos la investigación lo que va a concluir

transparente y objetiva y mis declaraciones se limitaron a exponer cuál eran el número de plazas que estaban en ese momento paralizadas sin ninguna minimización

lo cierto es que a día de hoy se han abierto cuatro expedientes de investigación en categorías médicas hospitalarias

actuó de inmediato y tomó la decisión de solicitar un análisis estadístico de coherencia de resultados a un experto independiente

junto a los sindicatos firmantes del acuerdo continuar con las pruebas pendientes al no apreciarse riesgos

se ha dado información también a todos los grupos políticos tuvimos una reunión con el ararteko

a disposición de la fiscalía ha habido reunión también con todos los colegios de médicos por lo tanto insisto

y exhaustiva tanto de los procedimientos organizativos como de las pruebas realizadas en esta ope

y se abrirán expedientes de investigación en cada uno de los que se detecte

somos los primeros interesados en que este asunto se resuelva cuanto antes y continuaremos trabajando y haciendo todo en nuestras manos para ello yo no voy a juzgar interpretaciones o no

sobre algo que lee en un periódico sobre unas declaraciones que yo hago en un sitio eskerrik asko darpón jauna

sí señor consejero pero mi labor como oposición obviamente es valorar las declaraciones que usted hizo y

las irregularidades que puedan estar sobre la mesa analizándose sin perjuicio obviamente de que puedan haber

posibles irregularidades pero además señor consejero el interés no es de este grupo que obviamente somos un grupo que

sino también por el buen nombre de osakidetza y también por la propia tranquilidad

personas que opositan que concurren y que tienen aspiraciones de tener una plaza en osakidetza y también por la propia tranquilidad del conjunto de la ciudadanía vasca

ayer señor consejero en este parlamento se llegó a un acuerdo importante que ustedes prácticamente aprobaron un acuerdo que

en un cambio yo al menos lo entiendo así y así lo entiende mi grupo de posición en relación a la actitud que hemos conocido en los días precedentes por parte del gobierno el acuerdo de ayer habla claramente

que se han vulnerado la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública insta al gobierno a llegar hasta el final creo que eso es muy importante que ayer quedara claro y haya un mandato de esta cámara al gobierno

en el traslado de las irregularidades a la fiscalía por lo tanto también transparencia

en la presentación del informe externo que se está elaborando en esta cámara y sobre todo finalmente también un punto que recoge que se tienen que establecer garantías en futuras ope para garantizar la transparencia y el principio de igualdad de oportunidad y en ese sentido la adopción de las medidas necesarias creo que ustedes

reconocen cuestiones que hasta hace poco negaban y eso creo que es un paso importante y creo que es un avance significativo y así lo valoramos y esperemos señor consejero que este acuerdo se cumpla que este mandato sirva para esclarecer de forma total lo que ha pasado y espero que usted dé las explicaciones necesarias y a las que sean requeridas en este parlamento también próximamente que como todos sabemos
se habilitará en el mes de julio para ello nada más y muchas gracias eskerrik asko

coincidido con algunas de las apreciaciones que ha hecho usted sobre la tribuna permítame que le diga el grupo parlamentario

ayer votaron en conciencia lo que creían que debían de votar no votaron a rebufo de nadie segundo

y lo sigo diciendo porque tenía mejoras importantes sobre otras y porque yo no voy a aceptar nunca de nadie

que trabajan en la plantilla estructural de osakidetza muchas con plaza en propiedad

por sus competencias y en igualdad de condiciones estamos muy cansados de repetir porque así creemos en ello de que

que ha habido en este país le han dado una financiación adecuada además de que los sucesivos

han tenido una planificación continuista sin hacer casi ninguna legislatura o ninguna borrón y cuenta nueva yo estoy absolutamente convencido

los mejores profesionales de que nuestros profesionales son mejor que la media de la mayoría de las profesiones sanitarias no del resto de comunidades

de salud del mundo porque además de la competencia técnica y buenos medios aúnan el compromiso con su trabajo con el servicio público de salud y con algo muy difícil de conseguir

en el sitio del que está enfrente por lo tanto coincida usted conmigo y no dude de lo que ha ocurrido antes y además usted ha apoyado ofertas públicas de empleo en otros momentos de otras legislaturas y estoy seguro de que en conciencia

bai egun on antes de dirigirme al consejero sí

nuestro más absoluto desacuerdo con la decisión de la audiencia de navarra de poner en libertad a los condenados en el caso

de la manada y ahora sí

aprobó una proposición no de ley transaccionada con los apoyos de los grupos nacionalista vascos socialistas vascos y populares

y con las diferentes administraciones vascas sobre la posibilidad de la implantación de la conocida tasa turística se rechazaba sin embargo en aquel mismo pleno la iniciativa original para instar al gobierno a realizar una propuesta concreta que permitiera que los ayuntamientos que lo consideren oportuno puedan aplicar esta tasa turística era el resultado de un debate que trajimos

desde mi grupo precisamente para instar al gobierno a que pusiera en marcha las medidas oportunas para que los ayuntamientos que así lo deseen puedan aplicar una tasa turística nuestra iniciativa no tuvo respaldo mayoritario en la votación aun cuando varios portavoces de quienes votaron en contra

sí eran favorables a la posibilidad de poner en marcha en algún momento esta medida casi todos los grupos se manifestaron abiertos a la posibilidad de que se ponga en marcha en algún momento la tasa turística los mismos grupos que gobiernan

que serían favorables al establecimiento de esta tasa pero en aquella ocasión se nos dijo que solo

mantener se podría o el gobierno vasco podría abordar la decisión sobre la tasa turística

hace tiempo una opinión clara sobre este tema somos partidarios y así lo expresé en aquella ocasión de poner en marcha la tasa turística

porque pensamos que la medida no es novedosa se lleva debatiendo y analizando durante muchos años sabemos y sabe usted perfectamente que en nuestro entorno esta tasa tiene una importante presencia desde hace tiempo en algunos lugares como parís por ejemplo se lleva aplicando desde los años noventa del ya pasado siglo

resultados no produce impacto negativo en el turismo de aquellos lugares en los que se aplica y permite una serie de beneficios económicos y de impacto social que pueden redundar tanto en el propio sector como en los gastos que el turismo genera en las ciudades

que más tienen este turismo gastos que ahora mismo soportan fundamentalmente las y los vecinos de los propios municipios

en nuestro caso hablamos de manera especial de la ciudad de donostia pero también de algunos otros municipios como zarautz hondarribia etcétera

de la tasa en aquellos municipios que más impacto turístico soportan en euskadi supondría por lo tanto una interesante herramienta en nuestra opinión para evitar que los gastos públicos generados por dicha actividad

en las vecinas y los vecinos de estos municipios que son quienes al final pagan tasas de residuos

etcétera no sé si usted conoce que en el caso de donostia por ejemplo estas tasas han ido en aumento estos últimos años las tasas sobre residuos un catorce por ciento desde el año dos mil quince es la tasa más alta de todo el estado español la tasa del agua en donostia ha aumentado un once por ciento también en estos años y el precio base del autobús urbano muy importante para quienes vivimos en los barrios obreros del cinturón de donostia

legislatura municipal en europa son mayoría los países que cuentan de alguna u otra manera con esta tasa turística usted lo conoce perfectamente se trata de una tendencia que se está generalizando a nivel mundial y que resulta de un gran interés debido a los beneficios económicos que pueda aportar al país

a las y los vecinos de las ciudades se trata de una medida conocida y aplicada con buenos resultados que está siendo solicitada por dos

de manera especial en el caso de donostia que lo ha solicitado en numerosas ocasiones a través de acuerdos del propio pleno municipal la última vez ayer mismo

de nuevo por unanimidad de todos los grupos volvieron a decir sí al implemento de la tasa turística y por lo tanto nosotros pensamos que el gobierno debería estar ya

de decir que comparte esa opinión que ayer expreso el ayuntamiento de donostia nuevamente y de decir que quiere que se pueda poner en marcha la tasa turística pensamos que el gobierno ya está en condiciones de aclarar si quiere o no quiere que en euskadi los municipios que lo estimen oportuno

pensamos que nueve meses desde que debatimos aquí en esta cámara ha sido un tiempo razonable para que el gobierno vasco haya hablado con diferentes agentes y haya podido aclararse sobre esta cuestión por eso hoy nosotros le interpelamos para saber si ustedes van a impulsar ya esta medida

aún más o que hay que seguir consultando con los agentes suponemos que las consultas

ya las han realizado ustedes en este tiempo y también nos gustaría señor consejero en caso de que el gobierno ya tenga clara la necesidad de esta medida

porque hemos podido escuchar este mismo mes opiniones encontradas sobre sí la medida

de la de gipuzkoa que es la interesada o bien por parte del propio gobierno vasco opiniones encontradas entre responsables institucionales o más de los mismos partidos los que gobiernan tanto en donostia como en la diputación de gipuzkoa como en la comunidad autónoma

institucionales de una manera más nítida porque además están compuestos por los mismos colores y por lo tanto no debería ser tan difícil el señor ernesto gasco teniente alcalde de donostia decía la semana pasada que un estudio

el señor retortillo concluye que al tratarse de un impuesto su implantación es competencia foral por lo que correspondería

en cambio fuentes de la hacienda guipuzcoana han explicado recientemente que la competencia de iniciar este es del parlamento vasco del gobierno vasco el propio portavoz foral de gipuzkoa imanol lasa ha dicho que el gobierno vasco desde la dirección de turismo ha elaborado un proyecto para posibilitar marcos legales

algo esto que ha dicho el señor lasa que por cierto es básicamente o sin el básicamente lo que pedíamos

es exactamente eso lo que pedíamos por eso le pregunto si esto es cierto decirle también parece que ustedes están acabando o quizás ya lo han acabado no lo tenemos claro un estudio sobre esta cuestión

ahora también parece que la diputación está haciendo un nuevo estudio no es el primero a nosotros nos parecen muy bien los estudios que se hagan

este asunto y que no se acaba de aclarar en este caso me refiero al gobierno vasco

o no nos gustaría saber si el gobierno vasco quiere que en euskadi exista la tasa turística y si la respuesta es sí nos gustaría saber qué van a hacer para que sea una realidad cuanto antes si la respuesta es no le trasladare en el segundo turno de intervención la intención de mi grupo de seguir insistiendo e intentando convencer al gobierno de que es una medida positiva de que se debería implementar cuanto antes lo que sí le pediría es una respuesta clara

que ya deben de tener ustedes los elementos suficientes con el trabajo que se ha hecho para tener clara la posición de si consideran oportuno que tengamos ya

de que los ayuntamientos que la creen oportuna la puedan implementar

gracias señora presidenta señorías señor

en cuanto a esta cuestión la cuestión sobre la tasa turística la llamada tasa turística

y que además lo he hecho públicamente mi posición al respecto primero

de hecho desde el punto de vista digamos conceptual sobre la tasa turística mi posición es favorable pero al mismo tiempo también he dicho

de gobierno esta posición debía ser

de euskadi como digo esto lo he dicho en varias ocasiones partiendo de esa posición favorable establecía algunos parámetros que me parecían básicos para centrar el debate el primero que la realidad del turismo en euskadi es

y que por lo tanto la posición favorable

no podía derivar en una aplicación de manera obligatoria e igual en todo el territorio

en función de esa situación heterogénea debía haber margen para que la decisión de implantarla fuera municipal aunque no la regulación que no les corresponde en segundo lugar la otra premisa que me parecía básica y que en ocasiones se olvida es la referida

la llamada tasa turística en la cual me parecía también necesario que había que reflexionar sobre ese destino porque no podía dejar de lado al propio sector que los genera ya sea en términos de promoción o infraestructuras porque le diré algo

a partir de la tasa turística solamente estamos hablando de un aspecto el de las estancias turísticas porque el sector turístico ya sean

el transporte etcétera etcétera tributa tiene una fiscalidad todos esos servicios tienen una fiscalidad que son ingresos que se generan desde la actividad turística para digamos para las arcas públicas todos esos distintos aspectos

sino de la referida a las estancias turísticas y la última precisión que hacía en relación a este debate es que

como un regulador o como un freno de la actividad turística sobre todo porque no funciona como tal es decir que si alguien pretendía establecer la tasa como una manera de regular el turismo regular el volumen del turismo me parecía que se equivocaba que el planteamiento fundamental debe ser

de esa tributación y a apoyar iniciativas de turismo sostenible ese me parecía que tenía que ser fundamentalmente el destino de esta tasa bien como usted bien ha dicho se aprobó una

por cierto hablando de tiempos la iniciativa de la pnl es de mayo de dos mil diecisiete

el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete decía que efectivamente digo al hablar de tiempo y al hablar de prioridades y de urgencias

efectivamente se insta al gobierno en la

por la importancia en función también de esa premisas que parecían de acuerdo también con las posiciones de otros

de la importancia de que fuera una tasa digamos de implantación municipal y que no correspondiera a todos los municipios una interlocución con eudel y por la otra que se contara también o se hablase también con el sector y con

tratar de avanzar en el análisis y la decisión sobre la implantación o no

desde el momento en el que se aprueba la pnl a parte de las intervenciones públicas que siempre

ya le digo que a nivel conceptual tengo una posición favorable a la tasa turística

tenía más o menos los parámetros claros y más aún al ver la realidad del turismo en euskadi

decía que desde entonces efectivamente he tenido contactos con el sector con

institucionales con aquellos que tenían que ver con el área de turismo con aquellos que tenían que ver con otras áreas en el nivel municipal también información de otros departamentos de gobierno y básicamente de hacienda

también con el sector a propósito de esta cuestión

en relación al primer punto que era el de la interlocución hacia febrero o marzo establecí

de eudel que la forma más adecuada para establecer una

sería establecer un foro específico no genérico de eudel sino específico con municipios o al menos con una representación de distintas tipologías de municipios en relación al turismo que permitiera digamos a los municipios interesados hablar y reflexionar

en ese mismo mes de marzo decidí puesto que efectivamente después de todos los contactos fundamentalmente y usted ha reflejado algunas de ellas en su intervención

tasa turística y en algunos aspectos que son claves a la hora de su implantación decidí encargar un informe experto sobre la tasa turística que hablase en genérico primero de cuál es la situación de la tasa turística en aquellas comunidades autónomas que la han implantado también en otros contextos europeos porque en algunos son normativas generales en otros casos son normativas específicamente municipales

cuál es el margen para establecer la finalidad de esa tasa

las competencias o el conflicto de competencias fiscales que pueda establecerse entre distintas administraciones cuál es el tipo impositivo porque hablamos todo el rato de tasa pero es un impuesto etcétera encargué en el mes de marzo un informe que está pronto a su finalización usted ha hablado de las discrepancias aparecidas en prensa últimamente respecto de lo que habría que recordar la máxima de mark twain cuando dijo aquello de que

exageradas se ha hablado de un informe pero usted no ha mencionado ninguna declaración mía porque ninguna declaración mía

y no ha habido ninguna porque el informe todavía no lo he recepcionado por lo tanto todos los que han hablado de conclusiones o de la existencia

y segundo es imposible materialmente porque el informe no ha llegado pero como le digo estará mis manos a finales de este mes qué pretendo hacer con ese informe convocar efectivamente ese foro específico de eudel para cuestión para reflexionar sobre esta cuestión una vez que tengamos información no de oídas ni de prensa ni de impresiones ni de debates en el aire

a la propia regulación en euskadi y al sistema competencial en euskadi eso con ese foro del que ya le digo ya hablé con imanol landa presidente de eudel para establecerlo

y también llevar después esas conclusiones a partir del análisis que yo mismo haga respecto de ese informe llevarlo también al sector a través de la mesa de turismo en cualquier caso y respecto de su pregunta sobre la posición o no posición que pueda tener este consejero

llevarla adelante con los ritmos que sean precisos teniendo en cuenta el primer aspecto que le dije sobre considerar la heterogeneidad y la finalidad de los ingresos pero sí le muestro mi propósito

de llevarla a delante una vez que además tenga esa información y hacerlo también obviamente en colaboración no solamente con las instituciones locales a partir de ese foro específico de eudel sino también con el sector

pero también le diré que me he encontrado con otras posiciones incluso municipales bastante contrarias
pero mi propósito es liderar la cuestión gracias eskerrik asko retortillo jauna

sí gracias por la respuesta señor consejero yo me quedo con su posición favorable aunque sea conceptualmente a la tasa turística

sostuvimos aquí el debate en septiembre del año pasado

favorables a esa tasa y por eso en aquella ocasión además dije que no entendía por qué no habíamos conseguido un acuerdo mayoritario sobre esta cuestión porque además el único grupo que al menos en esta cámara se opuso claramente fue el partido popular me quedo con eso

no sé si de aquí se puede interpretar que vamos a tener tasa turística en euskadi que con los parámetros que tenga que tener y es verdad que hay un amplio consenso en que sean los municipios interesados los que la puedan aplicar y aquellos municipios que no están interesados lógicamente que no la puedan aplicar porque tenemos varios municipios concretos

que lo llevan pidiendo de manera reiterada y que supondría para ellos y en especial hablo del caso de donostia supondría pare ellos un beneficio y sobre todo para la gente que vive

ciudad un importante beneficio ha hecho usted referencia a los tiempos yo ya lo dije la otra vez y sí se lo quería

y precisamente esperamos a septiembre de ese mismo año porque sabe usted que había en aquel momento un debate acalorado con el tema del turismo

que nosotros no queríamos que la cuestión de la tasa turística

no pretende cuando trae a esta cámara o cuando le interpela al gobierno sobre la tasa turística no busca que la tasa turística desincentive el turismo no lo que busca

una herramienta que en nuestra opinión sería más justa para la gente que vive en unas ciudades en este caso en donostia

duplicando el número de visitas de turistas y que eso genera como le he dicho antes que están subiendo los impuestos locales las tasas locales

muy importantes quince por ciento residuos once por ciento en agua eso para la gente en su día a día

y es muy bonito bajar al centro de donostia y verlo todo estupendo y ver a los turistas encantados con el excelente escenario que tenemos en esta ciudad

están sufriendo también estas cosas y no se trata de ir contra el turismo de adaptar el turismo con medidas que también eviten consecuencias negativas para la vida

también mayores desigualdades también pienso que ustedes por lo que me dice pues bueno tampoco me acaban de decir si sí o si no yo me voy a quedar

con el tema de la tasa turística pero sí que nosotros pensábamos que ya con todos los estudios que se han hecho con los informes que hay etcétera el gobierno debería poder haber sido un poco más nítido en ese sentido sobre todo si además usted como consejero tiene una posición favorable

en que no hay elementos para decir que quizás tal vez cuando tengamos los estudios acabemos concluyendo

es buena la tasa turística vamos a tener una tasa turística en euskadi pero vamos a hacer que la tasa turística sea adecuada a la realidad

sobre la cuestión de los destinos de lo que pueda recaudar esta tasa es verdad y nosotros estamos de acuerdo que una parte tiene que reinvertirse en una mejora del propio sector turístico pero nosotros vamos a seguir haciendo mucha incidencia precisamente en que pueda repercutir

de las ciudades para nosotros esto es muy importante y me parece que ambos destinos no son contradictorios ahora sí la opinión que tienen los empresarios del sector a nosotros nos parece que bien se tiene que tener en cuenta nosotros no nos vamos a oponer a eso pero también le pedimos que cuidado

tienen intereses de parte concretos legítimos pero tienen intereses de parte y hemos oído algunas declaraciones no de usted del señor denis itxaso en este caso diciendo que esto no se puede hacer sin digamos el voto favorable entre comillas de este sector hombre yo aquí sí les pediría cuidado hay que tenerles en cuenta pero aquí

señor hernández ya le he expresado mi compromiso en llegar hasta el final pero también con todos y por lo tanto permítame que no prejuzgue

y desde la responsabilidad del gobierno adaptada a la realidad de euskadi y por empezar por lo último creo que

también hay que contar entre otras razones por lo que le he dicho que la tributación del turismo no se limita solamente a esta cuestión de la tasa turística por estancia

la tributación también hace referencia a todos los demás servicios turísticos alojamientos transporte intermediarios turísticos etcétera que obviamente también tributan y dejan ingresos en las arcas por cierto una cuestión

la comprensión de la fiscalidad con que lo que yo genero me lo quedo yo

de que hay que pensar en el destino le estoy diciendo que el destino incluso en el ámbito supramunicipal porque considerados solamente el impuesto en términos de gasto local supone una visión del turismo que obviamente no comparto pero incluso de la fiscalidad

el problema es que se acaba deslizando ese tipo de interpretación sobre esta cuestión que por eso me parece tan importante la de que discutamos también cuál es el destino de los ingresos y respecto

cómo se dedican los presupuestos municipales al centro o a los barrios a la hora de cobrar obviamente esa cuestión también me permitirá que le diga que no se puede

de esa situación que esa es una situación vieja esa es una situación que afecta también a municipios que no tienen en absoluto

utilizamos la política fiscal para distribuir los ingresos también por ejemplo

en el ámbito local en cualquier caso en cuanto a los tiempos

registró la interpelación esta interpelación y solicita la sustentación de esta interpelación

y en este caso no me hablará que había una interferencia de movilizaciones le digo para que vea la cuestión de las urgencias yo ya sé que eso no es porque usted no ha trabajado

además del turismo que también tiene otras cosas a parte de esta tasa turística

pero obviamente entre las varias cuestiones que tiene el departamento precisamente por esa situación de indefinición no era en determinado momento no era la número uno había otras cuestiones a resolver que eran bastante más prioritarias le reitero mi compromiso de que efectivamente lleguemos hasta el final y que haya una discusión seria porque ha habido en demasiados

para que tomemos una decisión al respecto es obvio que no porque este estudio sobre el que se ha informado exageradamente como diría mark twain

ahora todo el mundo está esperando a ver ese estudio qué es lo que dice ese estudio y cuando digo todo el mundo le digo

distintos departamentos que de repente parece ser que no todo estaba informado y analizado porque me lo piden a mí ahora incluso desde el punto de vista de la prensa por cierto que esta cuestión también ha servido por lo menos por mi parte para corroborar que la post verdad no es una cuestión solamente que está en los libros y en los congresos sino que se practica en la información también

yo no hice declaraciones pero obviamente sí contesté diciendo que el informe no estaba y aun así

un informe como le decía inexistente lo tendremos a finales de este mes lo analizaré y como le digo llevaré esas conclusiones en primer lugar a eudel y en segundo lugar al sector

las conclusiones a las que vayamos llegando para ir perfilando esa tasa turística y la posibilidad de esa tasa turística y en qué modalidad y con qué destino etcétera en el caso concreto

el decreto de asistencia jurídica gratuita es la fórmula mediante la cual la administración asegura a todo ciudadano y ciudadana

fruto de la entrada en vigor de la ley de asistencia jurídica gratuita en el año mil novecientos noventa y seis en estos momentos está vigente en nuestra comunidad un decreto del año dos mil doce las modificaciones legislativas posteriores han aconsejado la elaboración de un nuevo decreto para adaptar las novedades normativas e incorporar mejoras mejoras para corregir disfuncionalidades observadas en la aplicación práctica como

tanto para la administración como para los colegios y personas profesionales que presten el servicio lo que se pretende con este decreto es alcanzar la máxima eficiencia del sistema de justicia gratuita y un mayor reconocimiento de los profesionales que la ejercen respondo directamente a su pregunta en qué situación se encuentra el decreto de asistencia jurídica gratuita en este momento se está analizando la necesidad de

las modificaciones que pudiera exigir la ley tres barra dos mil dieciocho de once de junio y que tendrá efectos el uno de octubre de dos mil dieciocho adaptaciones del proyecto viene en la memoria o en el articulado o en ambas si son necesarias porque esta ley modifica el artículo seis apartado tercero

de la asistencia jurídica gratuita incorpora un artículo el veintiuno bis sobre sustitución del profesional designado

y remitido a la cojua a la comisión jurídica asesora de euskadi para que elabore el informe correspondiente la remisión se hará a principios de la semana próxima

la muy reciente publicación de esta ley de tres barra dos mil dieciocho el decreto podría haberse aprobado antes de finales de este mes como ya se le había transmitido y estaba previsto no le voy a describir todo el procedimiento que ha de seguirse para

aunque sí puedo decirle que todos los informes preceptivos dan seguridad a la norma

con los operadores jurídicos y se han recabado informes del consejo general del poder judicial consejo vasco de la abogacía consejo de procuradores del país vasco y los colegios

en la propia administración se han recabado informes de la

también de la oficina de control económico y la cojua pendiente para dar esa validez jurídica

pero que nos da la seguridad de que ponemos al servicio de la sociedad una herramienta

consolida base legal en todo caso en este caso me interesa más el fondo desde luego que la forma y el contenido desde luego
pienso que es el adecuado eskerrik asko eskerrik asko

señora consejera con sus respuestas yo me suelo quedar entre estupefacta alucinada

superar para venir a dar contestación algunas cosas y le voy a decir por qué porque mire yo le hice una pregunta por escrito usted me respondió

supongo que cuando me dijo eso usted ya sabía que eran necesarios todos estos informes que me ha contado supongo que tenía conocimiento por el cargo que ocupa consejera de justicia

todas esas modificaciones y sabía que con todo eso o pensaba

en vigor en enero le pregunté y le interpelé y usted me dijo aquí puesta aquí que iba a entrar en vigor

en junio del dos mil dieciocho no ha entrado en vigor ni en enero ni va a entrar en vigor en julio y ahora tampoco me ha dicho cuándo porque ahora ya

yo le voy a decir una cosa señora consejera hay una cosa de primero de política y no le quiero dar lecciones y se lo digo con mucho respeto no prometas nunca

no prometas nunca lo que sabes que no vas a poder hacer y no está en tu mano no prometas nunca lo que sabes que no vas a poder hacer y tiene relación directa con derechos de las personas y en este caso

el derecho a la justicia gratuita tiene relación directa con todas esas personas que no pueden acceder a la justicia de otra manera tiene relación directa con las mujeres maltratadas tiene relación directa con cómo y de qué manera se quiere administrar la justicia

y no se va a hacer así y eso es un problema y luego yo encuentro otra cosa

que dice el mismo pasacalle que vamos por otra calle y aquí esto es exactamente igual el mismo pasacalle vayamos por la calle que vayamos el departamento hace todo bien lo hace todo perfectamente

pero cuando llega aquí a dar explicaciones no hay decreto no hay puntos de encuentro

que esto era una prioridad y se mostró orgullosa de la cantidad de dinero que se iba a destinar para esto pues tenemos un problema porque no hay decreto

hace que se retrase toda la tramitación no se va a poder hacer nada en el último trimestre de este año

las explicaciones las tendrá que dar usted señora consejera

van a tener sus derechos conculcados en este caso por esta actuación eskerrik asko

creo que ya le he dije en esta tribuna efectivamente que en julio iba a entrar en vigor

la ley tres barra dos mil dieciocho que nos obliga a hacer modificaciones pero que en todo caso

no de una tramitación de un decreto que implica a muchos departamentos implica a muchos órganos y que algunos agotan plazos otros piden ampliaciones y yo creo

y con respecto a eso decir que desde luego el decreto entrará en vigor en el tiempo más breve posible que será una vez revisado

lanzar un decreto y que haya que modificarlo nada más sacarlo eskerrik asko